el gobierno vasco en un esfuerzo presupuestario extraordinario logró que conjuntamente con la industria vasca una diversa red de centros tecnológicos que en no mucho tiempo adquirieron una relevancia a nivel estatal e incluso europeo esos centros tecnológicos unidos a los propios de la administración especialmente

que nos permitía presentarnos en el exterior de un modo relevante

esfuerzos en algunos centros tecnológicos concluyendo en la fusión de varios de ellos alrededor de tecnalia o el funcionamiento especializado y coordinado de i ka cuatro

tanto en el área administrativa con la aprobación en dos mil quince de un decreto para reordenar la red vasca de centros tecnológicos como todo el planteamiento ris tres

con preferencia en el plan de ciencia y tecnología e innovación aprobado la pasada legislatura estamos por tanto lo mismo que los ecosistemas de la naturaleza que evolucionan al estado de equilibrio madurez y máxima resiliencia

de reformulación de los centros tecnológicos y de la política de investigación e innovación donde parece que la especialización es el común denominador quizás quizás en ese camino se entronque el anuncio que hizo la semana pasada sobre los trabajos iniciados por el gobierno vasco para la creación de una nueva entidad tecnológica vasca que considere la totalidad de centros tecnológicos y los centros de investigación cooperativos pues bien por conocer con más concreción aquel anuncio

a efectuar esta modificación en las estructuras tecnológicas vascas así como qué objetivos busca y en qué plazo pretende efectuarlo muchas gracias eskerrik asko

desde las instituciones vascas hemos venido haciendo un esfuerzo importante mantenido por la investigación la innovación tecnológica el acercamiento al mercado la transferencia

modernizándolo y haciéndolo compatible con las necesidades actuales fruto de esta estrategia hemos modificado

cercana al mercado y excelente con esos objetivos

pero en estos momentos el núcleo principal en lo que se refiere a tecnología de desarrollo e innovación están trabajando en red es cierto están mejorando su estrategia pero queremos dar un paso más hemos puesto en marcha lo decía usted

en qué vamos a investigar en este país hemos modificado la situación de nuestros centros los hemos hecho más entendibles

reconocernos en el mundo necesitamos ser como otros países en los cuales existe una marca única con unos objetivos comunes con una atracción tanto de inversiones de proyectos europeos en este caso pero también de personas bien formadas que sepan cuál es su carrera profesional que gestionemos las patentes de una forma adecuada en definitiva

eficaz y que al mismo tiempo que permite la autonomía de cada uno de esos centros con sus objetivos particulares nos permita la colaboración mucho más efectiva y que las empresas sepan perfectamente a quién se acercan y qué servicios van a obtener con ese objetivo nos hemos puesto en funcionamiento esa entidad tendrá dentro de sí abarcará a los centros tecnalia research innovation y neiker los nueve centros de i ka cuatro y los cuatro en este momento por tanto son dieciséis centros dentro de esa única entidad

abordando su forma jurídica y esperamos que ya para junio del próximo año dos mil dieciocho podamos tener la marca en el mercado con una estrategia única de innovación y una forma de atraer a personas con una carrera profesional uniforme y a partir de ahí

esperamos tener todo el trabajo realizado estamos trabajándolo con los centros como lo hemos hecho siempre y vendremos a este parlamento a dar cuenta de los avances que se vayan teniendo eskerrik asko

solo hay una cifra aceptable de despidos en euskadi

es cero hay problemas asociados al mercado eólico hay problemas asociados al propio proceso de fusión o de absorción

y funciona con la lógica de esas multinacionales en el año dos mil dieciséis antes de la fusión gamesa sacaba pecho con unas cuentas históricas trescientos millónes de beneficio

dos mil diecisiete y su presidente ignacio martín decía gamesa después de la fusión

porque tenía su hoja de ruta y el viento a favor pero la empresa veía una oportunidad de consolidación importante

gamesa era una empresa estratégica por su valor tenía más valor en bolsa que todas las empresas industriales cotizadas vascas juntas

su peso en la red de proveedores del país y como empresa estratégica que era creemos que debería haber mantenido otra evolución porque convertirse en una multinacional le lleva a responder a la lógica de las multinacionales

cómo actúa a primeras de cambio una multinacional en el momento que empieza a bajar el valor en bolsa decide responder a los dioses del mercado a la antigua usanza

y aunque en euskal herria sea un número pequeño es inaceptable que una empresa actúe así cuando

otro tipo de actuación una empresa no olvidemos que cuando se produce la absorción se paga por parte de gamesa a sus accionistas un bonus

y después de haber ganado trescientos millónes en año dos mil dieciséis después

después de haber hecho ya un propio proceso de reajuste de plantilla en el año dos mil doce en gamesa que ahora se pretenda que por parte de la multinacional va a haber nuevos despidos es inaceptable las empresas vascas si tienen necesidades de financiación

deben tener recursos para hacerlo sin convertirse en multinacionales

enraizado en el país con conciencia y con responsabilidad social eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

en este momento decía tenemos ochocientos diez proveedores vascos de la compañía gamesa ha subido en el año dos mil dieciséis un veinte por ciento

pero a mí me interesa defender a nuestros proveedores y saber que van a continuar

hay un aspecto que sí me gustaría resaltar son la única compañía en este momento que está trabajando con todos sus proveedores en un proyecto de gestión avanzada para mejorar

y las oportunidades que tienen estos proveedores no actualmente solamente sino a futuro en la fusionada gamesa

eso supone que desde el gobierno vasco vamos a poder continuar colaborando con el clúster de energía

de esas mejoras que hay que introducir en nuestros proveedores hagan que esos proveedores sean competitivos

en ser un país competitivo y eso es lo que podemos hacer en este caso de la mano de gamesa porque tiene ese compromiso lo mismo podemos hacer con otras compañías sean locales o sean internacionales eskerrik asko

lehendakari jauna tiene previsto reunirse personalmente con trabajadores y trabajadoras

el gobierno está en permanente contacto con trabajadores con accionistas con directivos y posibles inversores también de manera ordenada

atendiendo directamente a cada necesidad concreta que se nos plantea

directivos trabajadores accionistas unidos en un proyecto común y le garantizo señor martínez que estamos en contacto con todos porque todos son importantes para sacar el proyecto adelante y le expliqué en el debate de política general cuáles son las fórmulas de trabajo que tenemos ante estas situaciones eskerrik asko

en nuestra opinión el gran problema que tienen usted y su gobierno precisamente es su falta de implicación con estas empresas en crisis esto se percibe claramente con el escaso o nulo entusiasmo que usted acaba

a la hora de ofrecer soluciones a los problemas de estas empresas porque son numerosas veces las que le hemos dicho ya que el punto débil de la política

y respuesta que dan ustedes a las empresas en dificultades

pero sobre todo se lo han dicho los propios trabajadores y trabajadoras y lo peor es que no lo corrigen no lo corrigen porque no tienen ningún interés

que es apático ante una crisis industrial que se está llevando por delante miles de empleos y decenas de empresas

para los miles de trabajadores y trabajadoras que se están viendo afectadas es un gobierno muy insensible al sufrimiento de miles de familias vascas que ven

son muchos los lugares en los que tiene que estar usted son muchos los lugares en los que tiene que estar el lehendakari

a su gobierno pero ninguno es tan necesario ninguno es tan inaplazable

como el de acercarse a las personas que sufren las consecuencias de sus malas políticas de políticas ineficientes de políticas que cuando no son capaces de revertir la situación son directamente responsables de que se haya llegado a ella como ha ocurrido en enkarterri con cel o en la margen izquierda con la naval o en bajo deba con o en edesa mucho más larga si hay un lugar en el que tiene que estar el lehendakari personalmente es dando apoyo a aquellas personas que ven cómo su futuro se les escapa de las manos en forma de un cierre injusto de su centro de trabajo y es que nunca hay tiempo en su agenda

para escuchar a estos trabajadores ni para mostrarles solidaridad o cercanía no han sido pocos los comités de empresa que se han quejado amargamente de la mala actitud de su consejera señor lehendakari

de este lehendakari no hay sitio para nada que no moleste a confebask

es a una consejera a la señora tapia hablando como si fuera la patronal o como si fuera la voz de la empresa y olvidándose en todo momento de reivindicar las demandas y las preocupaciones de las trabajadores y trabajadoras

es un gobierno de todos pero sobre todo es un gobierno de quienes lo pasan mal sabe usted de sobra que en política los gestos significan muchísimo

que el lehendakari es fuerte con los débiles y débil con los fuertes se les olvida a ustedes y se le olvida a usted que para reflotar una empresa en dificultades hace falta el compromiso de todas las partes y el primer y mayor compromiso es siempre el de las plantillas pero su respuesta es darle la espalda es ignorarlos y también es despreciarlos

a hacerse la foto en todas las inauguraciones pero nunca da la cara en los cierres de las empresas ya sé que me va a responder que hago populismo

y que no da la cara porque sabe que no puede mirar a los ojos a los trabajadores sin tener que agachar la mirada
euskadi no puede tener un lehendakari que no sabe ni puede mirara a los ojos al trabajador eskerrik asko martínez jauna denbora amaitu zaizu

nada de lo que ha dicho nada es verdad nada es verdad

la situación económica del apoyo a la empresa y el empleo es principal ocupación también del conjunto del gobierno no escatimamos esfuerzo ni tiempo y le podría contar muchas reuniones a las que he asistido no me citará usted

con cercanía y con disposición a buscar una solución un ejemplo hace una semana a esta hora visité una sociedad limitada laboral que ha superado una grave crisis y ha salido adelante también por apoyo del gobierno vasco en estos años de mandatos del lehendakari

estuve con los trabajadores y agradecieron el apoyo del gobierno allí remarqué el realismo y el compromiso con el que habían actuado todos reitero la empresa

y solo así desde el impulso interno pueden salir adelante desde el proyecto compartido el gobierno va a seguir priorizando el apoyo a las empresas

apoyamos la competitividad en los ámbitos críticos innovación internacionalización inversión generadora de empleo financiación cooperación o formación vamos a mantener todas las herramientas a disposición de las empresas con una actitud proactiva

que dan resultado y contribuyen a mantener actividad y empleo actuamos con realismo y con cercanía codo con codo con la empresa no niego las dificultades

y se ha creado empleo estamos en una economía de mercado abierta a la competencia mundial como se ha visto en la pregunta anterior empresas en crisis y en dificultades han existido existen y existirán y quien diga lo contrario es un ingenuo o pretende ocultar la verdad algunas empresas

de todos accionistas inversores directivos y trabajadores y el gobierno y el lehendakari hace lo que tiene que hacer acompañar ayudar colaborar

poner a disposición programas de ayuda dentro de la legalidad del marco europeo en suma implicarnos con el objetivo de sacar el proyecto adelante

eskerrik asko mahaiburu andrea señor consejero dentro de las diferentes comparecencias que hemos podido escuchar en torno

al área de vivienda nos ha dejado muy claro que por una parte están las políticas de potenciación del alquiler y por otra parte también están las políticas de rehabilitación de vivienda y regeneración

constituyen una parte muy importante de la ley de vivienda

en el año dos mil quince dos cuestiones tremendamente relevantes que son una prioridad también para los socialistas vascos nosotros ponemos muy en valor la ciudad construida

y por supuesto que dentro de esas mejoras están las mejoras en cuanto a la accesibilidad y también las mejoras en cuanto a la eficiencia energética por tanto la regeneración de áreas urbanas

tienen también un doble efecto primero el de mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas pero también por otra parte tienen como objetivo

es un recurso bastante escaso en nuestra comunidad habida cuenta de las condiciones orográficas que tenemos euskadi cuenta con un parque de edificios muy envejecido porque entre otras cuestiones durante el boom

se construyó mucho en un breve espacio de tiempo y ese parque de edificios se ha quedado envejecido y ya sabemos que eso es sinónimo de problemas de conservación

de carencias en cuanto a la accesibilidad en cuanto a la seguridad un mal comportamiento en materia de eficiencia energética que creo que es un objetivo el de corregir

departamento en otras palabras que esos edificios van a requerir de intervenciones de rehabilitación profundas muy significativas durante los próximos años y ahí resulta

de una colaboración interinstitucional que en esta cuestión resulta fundamental por qué porque para poderlo poner en marcha se requieren procesos de información procesos de acompañamiento y de gestión social en todas las intervenciones gestión de las ayudas que se puedan poner

instituciones por tanto se requiere de una implicación interinstitucional para simplificar para agilizar los trámites y para poder hacerlo posible por tanto mediante la coordinación entre agentes públicos entre agentes privados abordar de forma sostenida las intervenciones de rehabilitación de renovación de regeneración urbana de mayor entidad que nos permita también que les permita a ustedes poner en marcha proyectos de rehabilitación que abarquen no solo viviendas concretas sino incluso poder ir a proyectos de regeneración

resulta fundamental por tanto habida cuenta que nosotros apostamos por ese tipo de políticas y que su gobierno o nuestro gobierno también lo hace me gustaría saber qué medidas concretas tiene previsto llevar su departamento

la apuesta por la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación de áreas urbanas es un compromiso de programa de gobierno y forma parte de nuestra

en la que estamos trabajando en euskadi como usted bien decía tenemos un parque edificado antiguo el parque edificado más antigua del sur de europa

y el cuarenta y tres por ciento de los mismos están construidos antes

hay mucho trabajo por hacer y un buen ejemplo de todo esto

un histórico edificio de viviendas en el barrio de txabarri esa

no solo es algo factible sino rentable desde el punto de vista social y ambiental porque al hacerlo como usted bien decía evitamos consumir un recurso escaso en euskadi que es el suelo pero además invertimos en integración social

y empleo por eso uno de cada tres euros de nuestro departamento se van a dirigir a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana pero queremos ir más allá de los clásicos proyectos de rehabilitación aislada centrado

queremos abordar operaciones que abarquen ámbitos residenciales más amplios

y queremos hacerlo mediante la colaboración entre instituciones agentes públicos y privados y también

de fondos europeos con este objetivo estamos diseñando una estrategia dinámica y sostenida en el tiempo a la vez que estamos acometiendo ya actuaciones vamos a seguir impulsando el programa de rehabilitación del área de txabarri y el sol de sestao y estamos trabajando en el proyecto de eficiencia energética para el barrio de coronación en vitoria gasteiz

y txonta en eibar y además estamos en conversaciones con los ayuntamientos para iniciar el próximo año proyectos laboratorio en diferentes barrios

iñigo de loyola en irún la esperanza zazueta en lasarte oria

y de cara a años sucesivos hemos comenzado a contactar con otros ayuntamientos como llodio

y estamos abiertos también a otras iniciativas en esta dirección por supuesto seguiremos apoyando

de edificios en aspectos fundamentales como son la accesibilidad o la eficiencia energética pero insisto creo que debemos de concretar y concentrar esfuerzos en intervenciones más amplias de manzana

y eso por razones obvias porque permiten rentabilizar socialmente mucho más la inversión que las inversiones aisladas porque tienen

efecto demostración que a la vista de los resultados ánima

porque revitalizan barrios muy necesitados de inversión pública y favorecen de verdad la mejora de la calidad de vida y la integración social

no me dirá que no le traemos preguntas los viernes para su lucimiento político como la de hoy porque tiene usted de qué presumir sobre el primer año si en un año que ha tenido usted estabilidad política ha tenido presupuestos

un año en el que se han anunciado importantes inversiones para el país vasco por parte del gobierno de españa un año que fíjese la semana que viene se cumple el año y como si fuera un regalo de cumpleaños

la nueva ley del cupo y la actualización del concierto y eso es un espaldarazo importantísimo para el corazón de nuestro autogobierno por tanto entiendo que usted tiene que

quizás usted es más autocritico que yo y por eso le pregunto cómo valora usted su primer año eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor alonso la semana que viene todavía no dentro de quince días es el año que cumplimos como gobierno en cualquier caso

me pregunta de manera tan escueta que me parecería indecoroso

de manual diciéndole también de manera escueta que la valoración es positiva

pero en cualquier caso le digo que la valoración es positiva porque cumplimos con la palabra dada

de los quince planes estratégicos once están vigentes

y ocho de los veintiocho proyectos legislativos ya se tramitan en este parlamento el presupuesto del año dos mil diecisiete

dieciocho remitido a esta cámara y este presupuesto garantiza también los servicios esenciales recupera la inversión incrementa la dotación

innovación y el apoyo al emprendimiento garantiza también la estabilidad

de gasto y reduce la deuda hemos aprobado también el plan de reactivación económica y el empleo dos mil veinte los resultados son positivos euskadi crecerá este año el dos coma nueve por ciento dos décimas más de lo estimado ha crecido la industria fíjese que hasta ela en su propia revista reconoce que a pesar de salvo casos puntuales

en euskadi han crecido las exportaciones y el turismo y ha crecido el empleo en lanbide hay

por lo tanto hemos asentado las bases con espíritu de colaboración y de acuerdo hemos demostrado lo sabe usted que el modelo de desarrollo humano sostenible funciona no vemos necesarios giros radicales espero que tampoco usted valoramos lo conseguido

por lo tanto sin autocomplacencia una valoración positiva y consciente de lo que nos queda por hacer eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

por ciento hecho ya yo creo le voy a decir la verdad puesto en marcha ya

han sido ustedes incapaces en este primer año de abordar ni una sola de las reformas importantes que necesita euskadi ni en materia de educación ni en materia de nuestro sistema de protección social

demográfico las cuestiones que ustedes mismos también se marcaron y problemas que compartíamos todos ahí no hemos avanzado en las reformas

curiosamente es todo lo que ustedes pactaron con el partido popular por tanto ahí les ha ido muy bien y le ha ido muy bien también al conjunto de los vascos le voy a decir algo usted se fue

aprendió el valor de la estabilidad política porque es importante pero en su ausencia se presentó aquí una reforma fiscal se presentó una reforma fiscal que ahora ya entra en las juntas generales para su debate su negociación y su aprobación que no ha satisfecho a nadie carece de ambición gente de su partido dijo que eran solamente retoques

lleva a una situación anómala en la cual resulta que tenemos concierto económico lo vamos a fortalecer pero el concierto económico sirve a los vascos para pagar más que los de régimen común

hacer de euskadi un lugar atractivo para la inversión y por tanto potente también de la creación de empleo empleo que en el tercer trimestre según la epa pues ha tenido malos resultados en euskadi porque subió el paro

naturalmente comparto su afirmación de que queda mucho por hacer

a todos a su gobierno al que no le deseo el fracaso y al conjunto de la sociedad

político y por eso yo le reitero que tenemos el compromiso para el dialogo y la colaboración que trabajamos para enderezar el entuerto y para arreglar el desaguisado

y que el año que viene puede ser un buen año y puede ser un año de estabilidad política pero para que eso pueda ser así se lo voy a decir con claridad necesitamos que usted se implique y necesitamos que usted ejerza su liderazgo porque básicamente depende de usted que las cosas

el próximo año que tenga usted estabilidad que tenga su gobierno capacidad de abordar las reformas que tienen pendientes y que no han sido capaces de encauzar en un primer año y por tanto de que demos buenas noticias y euskadi sea un lugar atractivo

no se vaya a canadá las próximas semanas esté aquí trabajando con nosotros y le aseguro que si usted ejerce su liderazgo las cosas pueden salir bien

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor alonso también desde canadá se puede trabajar por euskadi

en cualquier caso le veo a usted bastante autocomplaciente también en aquellas cuestiones que usted se apropia para sí en relación a los acuerdos con el gobierno vasco bien

iniciación de las obras del hospital universitario de araba en gasteiz

los nuevos servicios en el hospital urduliz oficinas en londres línea tres metro centro de fabricación avanzada aeronáutica tres centros de investigación universitarios centro de salud de amurrio y amorebieta banco de leche materna ertzain etxea de ondarroa plan de ciencia tecnología e innovación

centro de ciberseguridad acuerdo con dinamarca y con quebec ofertas públicas

los servicios de salud educación y seguridad podría seguir en aquello que es propio del gobierno vasco me habla usted de la materia fiscal ya se lo respondí también

en el anterior pleno de control que usted me planteó también esta pregunta

pero no tenga usted ninguna duda de que estoy implicado también en esa cuestión

mire hemos firmado el acuerdo de concierto y el cupo con el gobierno español que garantiza quince años de paz financiera y fiscal

eta se ha desarmado y sus presos han aceptado las vías legales de inserción que planteaba este gobierno hemos aprobado los informes sobre transferencias pendientes y espero que el gobierno español

tal y como reclama esta cámara tenemos tres años por delante y mucho por hacer mantenemos la prioridad de generar empleo y reducir el paro por debajo del diez por ciento y esa es una de las prioridades de este gobierno y en ello me implico eskerrik asko

esaldia izan zen que el gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales

hoy quiero en primer lugar darle la bienvenida a la defensa del autogobierno vasco construido hasta ahora no me equivoco verdad no me equivoco y además volver a recordarle que la respuesta se encuentra aquí en este parlamento señor urizar

acepte que hay muchas cosas que podemos hacer juntos podemos

en este momento en el que es cierto parece justificarse por determinados representantes una pulsión recentralizadora por parte de los poderes del estado usted me interpela y yo le sugiero que se sume a estos compromisos defensa y reclamación del autogobierno reconocido

y nuevo marco jurídico político y actualización del pacto estatutario por qué no estos compromisos y las cinco iniciativas que le he propuesto forman parte de nuestro programa de gobierno

por lo tanto tenemos margen para avanzar desde el acuerdo sin vetos sin exclusiones poniendo nuestro máximo esfuerzo en aunar voluntades y no en enfrentarlas

la aspiración colectiva que mejor responde al momento político que vivimos gure partetik dugun konpromisoa argi eta garbi aurkeztu dugu

oinarri eta printzipio zehatzei buruz usted señor urizar parece escuchar sí las palabras y ecos del exterior no sé si más que las palabras y ecos de este mismo parlamento o que a la propia ponencia de este parlamento de la que forma parte la ponencia de autogobierno está en marcha

es necesario respetar los foros y los plazos es necesario avanzar sobre seguro con espíritu constructivo y voluntad d acuerdo interno entre diferentes

mejor acuerdo esa es mi intención

no hay herramienta más poderosa para superar hipotéticos límites señor urizar no hay herramienta más poderosa que un acuerdo interno
con un amplio consenso en esta cámara y que cuente con la ratificación de la sociedad vasca eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urizar jauna zurea da hitza

de este propio parlamento vasco he afirmado nuestro respeto a las decisiones de las instituciones catalanas como lo hicimos ayer

estas premisas forman parte de nuestra propuesta de futuro para el autogobierno se lo repetiré una vez más yo creo en la vía vasca

trabajo en propuestas políticas he planteado el modelo de europa como federación de naciones y así lo voy a proponer en el documento de la visión vasca ante el futuro de la unión europea que he comprometido

de una directiva de claridad en la unión europea que sirva de paraguas a los estados miembro para facultar a las naciones sin estado que la componen a organizar un referéndum pactado cuyo resultado implique la apertura de una negociación

voy a seguir trabajando por esta propuesta anticipada por la declaración de barcelona

permite ofrecer una salida realista responsable adecuada y duradera a un conflicto de naturaleza política como es la crisis del modelo de estado y no solo en el estado español voy a trabajar por un nuevo pacto que dé respuesta a la crisis del modelo autonómico y asiente la realidad plurinacional del estado

articular una nueva división territorial del poder judicial posibilitar la proyección exterior y la capacidad de euskadi para intervenir

institucionalizar las relaciones en el territorio del euskera garantizar la bilateralidad efectiva de forma que el pacto no se pueda modificar unilateralmente por una de las partes voy a seguir trabajando por atender y por asentar las relaciones

la bilateralidad con garantías voy a seguir contribuyendo a la actualización del autogobierno vasco y su adecuación a la nueva realidad europea y del estado

de las soberanías compartidas en el marco de la unión europea beraz ondo dakizunez pertsona askoren lanari esker herri honek erakundeetan

egun on guztioi señoras y señores de gobierno vasco señor lehendakari en el que ustedes dicen que es el mayor presupuesto de la historia

lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi actualmente realizamos un proceso de mejora y actualización de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social

con profesionales y personas expertas en inclusión social que está reflejado en el documento de bases para la mejora de la renta de garantía de ingresos entre otros aspectos para la elaboración del documento se tenían en cuenta la regulación de las prestaciones de garantía de ingresos en otros países y comunidades autónomas

en cuanto a la prevención y la reducción de la pobreza el objetivo de dicho informe es doble presenta el diagnóstico específico del departamento

el último informe del ministerio de asuntos sociales sobre familias infancia y servicios sociales en su página cincuenta y dos dice que euskadi invierte cuatrocientos ochenta y ocho coma tres millónes de euros

y una de las cuantías más altas de europa otro informe elaborado por este gobierno describe la pobreza relativa en euskadi que comparada

y que la situación mejora gracias a nuestro sistema de protección en dos mil dieciséis la tasa de pobreza real de euskadi pasaba del nueve coma cinco al cinco coma ocho por ciento en la noveno legislatura la rgi se redujo un siete por ciento debido a la fuerte crisis y los salarios también se redujeron

hoy situada en términos razonables dada la situación del mercado de trabajo los datos indican que sí ya que ha permitido mantener tasas de bienestar similares o incluso superiores a muchos países del centro y norte de europa no cabe duda

a riesgo de destruir los incentivos al empleo ya que estas prestaciones han de suponer una ayuda o estimulo de acceso al mercado laboral en un análisis comparado con la existente y con la experiencia de noruega resulta que el nivel de nuestra rgi

un cuarenta y dos por ciento de nuestro salario medio cuando el de noruega suponía solamente el veintiocho por ciento

el veintiséis de octubre del año dos mil once la agencia efe decía que el gobierno iba a modificar la ley

aseguraba que eso era una medida transitoria y obligada por las circunstancias desde el gobierno se destacaba que los presupuestos para dos mil doce necesariamente austeros

que sin embargo se ha venido manteniendo todos estos años con crisis y según ustedes sin crisis todos estos años llevan ustedes perpetuando una injusticia hasta hoy

que son ya demasiados años haciendo que sean las personas más precarias las que están pagando las consecuencias de esa crisis

nos presentan unos presupuestos como los mayores de la historia del gobierno pero parece que no lo va a ser para estar personas consideran que esto es justo para el año dos mil dieciocho

nominal crezca un cuatro coma tres por ciento y subiendo y no hay posibilidad de que ese incremento revierta también al parecer en reducir un recorte que además de injusto en palabras de sus socias de gobierno fue temporal y era una medida transitoria una medida de esa crisis que según ustedes ya ha pasado pero que desde luego no ha pasado para todas las vascas y vascos

un recorte injusto llevan ustedes cinco años mirando a otro lado porque como el recorte se lo hicieron otros

no quieren asumir las responsabilidades que aun compartid desde luego es suya les parece que es coherente

que se niegan a reducir un quince por ciento el salario de altos cargos que superan los sesenta mil euros anuales mientras mantienen un siete por ciento a quienes

no es cosa mía no es cosa de elkarrekin podemos les voy a recordar palabras

en este mismo parlamento no es justo ni ético que sean las personas más débiles las que soportan las perores condiciones en los momentos de crisis ez da

y en todo caso superada la crisis para quién hay muchas personas que aunque ustedes no quieran o no les interese verlo dentro de ella personas a las que les estamos recortando un siete por ciento en sus ingresos ustedes señoras y señores del partido nacionalista lo quieran reconocer o no hoy

de que sus socias de gobierno en el año dos mil doce de la mano de la señora mendia la señora zabaleta y el ex lehendakari patxi lópez recortasen un siete por ciento a las personas perceptoras de prestaciones sociales

pero sobre todo responsables de continuar aplicando un recorte mezquino entonces y aún tantos años después en una

absolutamente injusto de verdad pueden decir hoy en este parlamento que sería un sobrecoste inasumible

al contrario genera y profundiza o puede generar y profundizar en brechas de desigualdad y esto es justo lo que ustedes están haciendo continuando con esta medida

sinceramente señoras y señores del gobierno debería darles vergüenza

entendemos es que las políticas que este gobierno y los anteriores han puesto en marcha han beneficiado a la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad

tuvimos esta semana pasada de la comunidad de castilla la mancha pero ellos mismos reconocieron las bondades el esfuerzo que este gobierno y que todos es de

con la que nosotros estuvimos trabajando porque ellos vinieron a aprender del modelo tanto de ley de garantía de ingresos y prestaciones como de lanbide para poner e implementar en su comunidad autónoma

nosotros estimamos que el proyecto de presupuestos para el año dos mil dieciocho garantiza que en euskadi la protección a las personas en situación de vulnerabilidad la situación de nuestra comunidad es positiva en relación al resto de las comunidades del estado y esto ustedes lo tienen que reconocer es un dato objetivo

esta cuantía es superior en términos de poder de paridad de compra en la cuantía garantizada tanto en francia con cuatrocientos veintinueve como en alemania con trescientos cuarenta y siete

por tanto consideramos que la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía que se encuentra en situación vulnerable está garantizada con la

miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren

y creemos que la política debe de servir para responder a las necesidades de la ciudadanía venimos aquí para mejorar las condiciones actuales venimos aquí también para hacer realidad un futuro mejor venimos aquí para hacer realidad un país compartido y hoy esa es la base de esta interpelación señora tapia azken

un medio los medios de transporte públicos que también creemos que tenemos que hacer mucho más atractivos sobre todo para hacer frente al automóvil entre otro por razones ecológicas

el transporte en su conjunto supone el treinta por ciento de las emisiones del

por eso cuando en octubre de dos mil quince y cuando se realizó la reunión entre el alcalde de gasteiz señor urtaran con el lehendakari señor urkullu y cuando

diferente al que se había anunciado antes de entrar se acordó un planteamiento para finalizar la línea de tranvía norte sur

la verdad es que en ese momento el único grupo que valoró positivamente la propuesta

desde luego coincidía en nuestro caso con la visión estratégica que tenemos para la movilidad también voy a recordar que en aquel momento al partido socialista le parecía una escusa lo que se planteó

yo voy a reconocer y me da pena que no esté en estos momentos como lo hicimos entonces la iniciativa de la entonces consejera señora ana oregi

porque la verdad es que creemos que es una apuesta muy interesante para la movilidad urbana

o buses eléctricos o azkar bus como los llamamos nosotros de última generación

muchos los califican como tranvías con ruedas de caucho y pueden competir en funcionalidad con el tranvía desde luego entre las ventajas podemos encontrar que supone un avance sin electrificación en transporte

comparados con los del tranvía y además pueden diseñarse al mismo nivel que el tranvía en cuanto a capacidad operatividad y comodidad no me voy a atrever a decir que no contamina

y si todas nuestras fuentes de energía fueran renovables pues podríamos decir eso

todavía nucleares y térmicas pues lo de que no contamina lo vamos a dejar para otro día

porque también aquí creemos que ustedes saben que para avanzar como país no van a poder contar con los del impuesto al sol

también se va a hacer en la línea de mayor afluencia de viajeros la que une más barrios de la ciudad y se conecta con el mayor número de líneas y por tanto de medios va a ser una apuesta para la intermovilidad un auténtico escaparate además para toda la ciudad que creemos que con este cambio también se van a optimizar tiempos en los recorridos

porque además tiene y debe de servir para facilitar la extensión de este medio de transporte a otras ciudades a otros municipios en cuanto al planteamiento técnico

eh bildu no estaba de acuerdo también en aquel momento era con el planteamiento de financiación del proyecto

de unos cuarenta y uno coma seis millónes la obra civil que se planteaba en aquel momento unos ocho coma seis millónes la adquisición de once vehículos y un coste previsto de mantenimiento

la suma si actualizamos los costes de mantenimiento se cifraría en un coste total de unos sesenta y ocho millónes de euros sin embargo la propuesta de financiación que se puso sobre la mesa se basaba en la colaboración público privada y suponía que una empresa adjudicataria costease las obras la compra de vehículos y el mantenimiento a cambio de un canon anual

si multiplicamos los siete millónes de euros por los quince años el coste del proyecto es de ciento cinco millónes la comparación

es algo con lo que euskal herria bildu no está de acuerdo y es lo que planteamos también en todas las instituciones

el dinero público es el de todos los ciudadanos y ciudadanas y creemos que hay que ser muy rigurosos en la gestión en esto tampoco nos gusta seguir el ejemplo de madrid ni sobre costes

por lo tanto no podemos también sino congratularnos en que fue posible encontrar el acuerdo y que usted señora tapia anunciase en febrero que la financiación sería pública y que la gestión

desde luego nos congratula el ahorro que supone a todas las instituciones y a todos los ciudadanos y ciudadanas pasar de casi ciento uno millónes de euros a sesenta y ocho creemos que es un gran avance ahora nos toca poner sobre la mesa otra cuestión pendiente y es la que afecta al tráfico de la ciudad dado el impacto que va a suponer el paso de este azkar bus o bus express por la rotonda de américa latina que como usted sabe es el punto negro de la ciudad

respecto a la propuesta que se nos hacía de obra civil aparecía en todas las calles que se planteaba hacer y sin embargo respecto

no disponemos de la nueva memoria técnica pero lo que sí podemos o lo que hemos podido hacer es el cálculo en base a las dotaciones presupuestarias que contempla tanto el gobierno vasco como el ayuntamiento como la diputación

una nueva rebaja respecto a los sesenta y ocho millónes de euros previstos en febrero con lo cual vemos dos opciones vemos que primero se han optimizado los costes también el coste y desarrollo de la tecnología nos permite optimizar luego nos parece además muy positivo pero vemos que tenemos

ante la disminución de costes que se plantean que creemos que va a ser positivo se nos abre también

y eso es lo que le queremos preguntar queremos conocer cuáles son las intervenciones previstas en el entorno

además teniendo en cuenta que se le ha venido solicitando desde diferentes voces del ayuntamiento entre las que se incluye euskal herria bildu

municipal que se haga frente al soterramiento o a parte del soterramiento del trafico teniendo en cuenta la afección del nuevo medio de transporte brt en la zona de américa latina

egingo dugun realmente para nosotros efectivamente era un proyecto interesante retomar el proyecto que se había presentado el año pasado poner encima de la mesa

de una electrificación del transporte por tanto ganábamos en dos aspectos conseguir una alternativa a un tranvía que realmente tiene unos costos elevados y además necesita una demanda elevada y en segundo lugar poner sobre la mesa también un transporte algo diferentes más vamos a decir porque como usted bien ha dicho

mucho más verde que el que tenemos en un autobús tradicional y desde luego que tenga otros parámetros de

que nos permita hacer que ese transporte sea algo diferente y que sirva además de ejemplo en otras ciudades

en diversos proyectos menores vamos a decir que desarrollan cada uno de los aspectos por una parte está la urbanización y creo que usted hacía referencia básicamente a este proyecto y se ha analizado todo lo necesario para hacer la reinserción urbana del autobús eléctrico

se ha analizado las modificaciones en viales y en rotondas necesarias para sustituir esa línea dos los servicios afectados

la urbanización en el entorno afectado porque en algunos casos el introducir una nueva parada o el introducir este tipo de autobús

y en definitiva un proyecto completo de todo lo que hay que poner en funcionamiento

con los técnicos municipales de acuerdo con sus solicitudes de acuerdo con lo que aparecía en el proyecto y una de las principales preocupaciones de todas las administraciones

observe que el proyecto es beneficioso y que todos aquellos ámbitos en los que hayamos interferido sean mejorados eso es algo en lo que todos estamos trabajando ese proyecto a día de hoy sin cerrar todavía insisto porque todavía estamos esperando los últimos detalles de

las paradas porque también afecta mucho el estudio que se ha realizado recoge la definición de la tipología de paradas de cómo se introducen en la ciudad

qué tipos de paradas se van a introducir hay dos tipos de parada distintas con

reducidos integrando elementos para expender billetes para validarlos integrando elementos de información y desde luego integrando esas unidades de recarga rápida que nos permita garantizar que el autobús va a funcionar siempre aunque se produzca algún problema

se ha además analizado propuestas del propio municipio que también afectan

como son el que se coloquen los andenes enfrentados en la medida de lo posible

de este autobús en el propio carril de tal manera que sea un carril exclusivo y que no haya interferencias

la prioridad semafórica que se mantenga la acera independiente de la parada es decir que las personas puedan circular de una forma adecuada o que el acceso

en la medida de lo posible no siempre es posible y que además siempre tengamos en cuenta que esas paradas sean absolutamente

bien garantizadas las pantallas de información serán de veintinueve pulgadas la iluminación será con led bueno en definitiva una serie de aspectos que perfectamente acordados con el ayuntamiento y que en este momento rondan alrededor de los diez millónes de euros diez coma tres concretamente sin cerrar también este proyecto en cuanto a la recarga eléctrica se han analizado de diferentes tipos de opciones y la que se ha adoptado es la de la carga mediante pantógrafo invertido es decir tenemos como una especie de ele sobre alguna de las paradas y en esos puntos se va poder producir la carga

dos cargadores por línea dos por cada sentido de circulación por tanto y aseguramos el servicio incluso en condiciones que haya fallo en los sistemas de carga bueno se ha analizado además

una vuelta completa en cada una de las líneas con esa recarga y que la recarga dure no más de cuatro minutos en cada momento de tal manera que no se produzca un retardo en el autobús se ha analizado evidentemente la potencia necesaria y todo lo demás y se ha considerado que

son de dos tipos va a ver siete de dieciocho metros y seis de doce metros de acuerdo con la solicitud del ayuntamiento también puesto que son ellos los que conocen

de viajeros en estos momentos la ubicación de los cargadores también de acuerdo con el municipio el propio ayuntamiento se ha establecido en dos puntos el bulevar y en mendizorroza de tal manera que tampoco afectemos

y la carga lenta evidentemente se producirá en cocheras como estaba previsto inicialmente también las nuevas tecnologías como usted dice han permitido reducir también los costos y

para esas unidades de recarga y después evidentemente tenemos todo lo que son venta y cancelación en paradas tal como

se va a realizar en el exterior no en el interior de los autobuses sino que así como las paradas van a tener una similitud con las del tranvía también la cancelación de títulos

de comunicaciones y venta y cancelación de títulos va a suponer alrededor de dos millónes de euros y por último señalización y comunicaciones

y que las comunicaciones estén perfectamente adoptadas todo ese sistema de validación

todo ese sistema de telemando y control van a ser alrededor de otro millón uno coma dos millónes de euros y por último

y seis de doce metros con un presupuesto aproximado de nueve coma cinco millónes de euros eso hace que el proyecto

si fuéramos a sacarlo a licitación en qué estamos en este momento en la ultimando los detalles de cada uno de los proyectos de acuerdo con las exigencias tanto por parte del ayuntamiento como por parte de tuvisa que va a ser el operador de toda esta infraestructura

de licitación de este proyecto de tal manera que ya el próximo año se puedan iniciar las obras por tanto yo creo que cumplimos con los objetivos que nos habíamos planteado y

interinstitucionales con ayuntamiento y diputación y quiero insistir en que esa plaza de américa latina puede tener problemas pero los tiene ahora

lo más efectiva posible lo más eficiente y que cumpla con las expectativas de la ciudadanía de vitoria gasteiz eskerrik asko tapia andrea larrion andrea zurea da hitza

que hoy me parece que viene bastante a colación y es una frase de bertrand russell que dice que los científicos se esfuerzan en hacer posible

imposible lo posible yo hoy le voy a proponer señora tapia en que hagamos posible lo posible

claro que estamos de acuerdo con el principio de los planteamientos técnicos creo que sobre eso no ha tenido duda en ningún momento y además efectivamente creo que hemos coincidido incluso en el estado en que nos encontramos en la curva de aprendizaje de la tecnología que además lo que ha posibilitado también una disminución de costes

también le voy a reconocer que no es esta la forma ideal en la que me gustaría tratar este tema con usted y creo que lo ideal hubiera sido además y lo hemos solicitado en reiteradas ocasiones

también dentro de la propia institución del ayuntamiento lo de que vayamos conjuntamente con la nueva demanda que tenemos

muy probable pero por lo menos podría ser posible a falta de ese acuerdo entre todos los grupos sí que se ha planteado al menos en las instituciones donde estemos hagamos un planteamiento conjunto

hace tres semanas les parecía bien hace dos semanas es cierto que no hemos podido tener esta reunión con usted la cuestión que traigo aquí y creo que será posible dilucidar aunque

es que en principio y eso se lo he dicho en la primera interpelación nosotros tenemos la memoria anterior no tenemos la nueva memoria y en base a esos datos le he comentado y creo

en principio un carril propio y tiene prioridad semafórica por lo que en estos momentos es previsible a falta de haber leído

que vaya a influir en el punto que en estos momentos es el punto negro del transporte en la ciudad de vitoria gasteiz es el punto más negro de la ciudad y en un punto en el que pasan setenta mil vehículos al día

tranvía peatones bicicletas y se le va a sumar el azkar bus y es lo que le decíamos que en el estudio anterior no veíamos cuál iba a ser la afección

no podíamos conocerla pero que es un tema que preocupa a la ciudadanía está claro el proyecto más votado el dos mil dieciséis para la realización de proyectos hay una convocatoria fue precisamente estudiar la viabilidad del soterramiento del tráfico en esta rotonda esta rotonda que como bien dice la afección actual ya es la que nos preocupa porque además también está en las inmediaciones de la estación de autobuses

es decir tenemos el problema sobre la mesa y creemos cuánto puede ir a más sabemos también porque eso es así que en el ayuntamiento se está realizando el estudio del soterramiento también sabemos que esto

que se instaló en dos mil cinco debajo pero también sabemos que hoy por hoy en ingeniería civil

y lo que planteamos aquí precisamente es cómo acometer en su integridad dentro del proyecto al nueva afección por la resolución de un problema que hay los responsables municipales ya estiman es lo que nos han dicho ellos el coste de esa posible obra en quince millónes de euros en función de que se pueda soterrar un carril o sean dos

ahora el de plantearlo porque y en eso acertamos tal y como nos acaba de anunciar todavía no se ha procedido a licitar las obras con lo cual todavía es posible plantear una ejecución conjunta de todas las obras que además no supongan para nada un retraso en el proyecto

que no se retrase la implantación del brt y sí se pueda acometer la reforma necesaria de la rotonda de américa latina hay un mal casi endémico yo no sé si es

una vez se hace para la sustitución de un colector luego se abre para la fibra óptica se vuelve a abrir y además este tipo de acciones provocan muchísimo rechazo y hastío en la ciudadanía además que este proyecto por cómo están ocurriendo otros va a estar bajo el microscopio y nosotros lo que planteamos es que lo hagamos bien desde el principio hay un momento para incorporar esas cuestiones y ese momento es ahora el recrecimiento económica para hacer posible el soterramiento desde luego en américa latina es un compromiso que euskal herria bildu va a llevar adelante desde luego en los presupuestos que se plantean aquí de gobierno vasco pero en el resto de instituciones también creemos que es el momento de hacerlo creemos además

en conjunto y que hay que hacerlo ahora y usted hablaba también de que este autobús o este bus exprés va a ser inteligente yo esta semana había la reunión de las smart cities y quisiera recordar aquí la frase de que no necesitamos

lo imposible posible un poquito creo que el arte de hacer posible lo posible

por tanto ahí seguro que nos va a encontrar en cualquier caso sí sigo pensando que esto es realmente un debate municipal el tráfico en una ciudad en cómo queremos gestionarlo en qué tipo de modelo de ciudad quiere gasteiz en este caso ser

qué tipo de circulación se tiene que dar si tenemos que introducir elementos de inteligencia que doten de inteligencia que nos permitan gestionar mejor porque al final el que el autobús sea inteligente o que la ciudad sea inteligente es para gestionarla mejor y hacerla más cómoda para las personas eso creo que lo compartimos también

y muchas otras cosas que probablemente también aparecerán además de esta plaza de américa latina pero también no estoy de acuerdo en otra cosa en que si se hacen

a la ciudadanía otro tema es todos los aspectos de urbanización de afecciones que se puedan producir se están tratando con el equipo municipal y con los técnicos municipales por tanto

dar el debate y a partir de ahí traerlo al convenio en el que estamos trabajando y a la mesa interinstitucional creo que es la forma en la que deberíamos hacerlo y que no nazca de un parlamento que no tiene en ningún momento ningún tipo de atribución en política municipal por tanto yo creo que es algo que tenemos que hacer algo que tenemos que hacer de una forma adecuada y algo que usted que está en el ayuntamiento de gasteiz tienen que hacerlo allí considero

que tenemos que ser eficientes como usted bien decía en el uso de los recursos públicos si ve realmente qué tipo de actuación hay que hacer y probablemente

que puede cumplir una función bastante adecuada por tanto vamos a intentar

de acuerdo con los técnicos municipales con el gobierno municipal y ver si en esa mesa interinstitucional encontramos una solución sin olvidarnos que esto es

gestión de una ciudad y competencia municipal cien por ciento porque también usted me podría decir que cuando se han hecho obras en el metro y me lo podía haber dicho hemos mejorado algunos

urbanísticos que han quedado de alguna forma con mejoras susceptibles de hacerse que no eran competencia del propio metro o en el caso

que no eran competencias propias pero que han sido una mejora y ese tipo de actuaciones también las vamos a hacer en el caso de la implantación del bus eléctrico y se hicieron con el tranvía pero creo que

de una mejora por las dimensiones que tiene por tanto vamos a trabajarlo

en el municipio en el ayuntamiento y a partir de ahí lo analizamos en la comisión interinstitucional
pero siendo conscientes de cuáles son las competencias de cada uno y cómo tenemos que ejecutarlas eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señores consejeros consejeras señorías señora consejera

para las diferentes actividades relacionadas con la mar y desarrollar aquellas actuaciones derivadas de dicha competencia

aquellas personas interesadas en adquirir una preparación adecuada a las exigencias del mercado de la mar competentes señora consejera para impulsar la formación en materia de diversificación

competentes señora consejera para impulsar la coordinación interdepartamental y con el sector de la mar para el diseño de la formación de la oferta formativa reglada la continua y los certificados de especialidad y la pregunta es cuál es el criterio del departamento a la hora de ofertar los cursos de certificados de especialidad

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de ocariz las necesidades formativas de la flota pesquera

vienen derivadas de obligaciones establecidas en diferentes marcos legislativos algunos de ellos corresponden a nuestra administración y otros no porque tenemos la dirección general de marina mercante que están en el ministerio de fomento

que son del ministerio de la seguridad social y evidentemente los que nos competen en este caso como departamento dentro de la dirección que usted hacía referencia

de euskadi la detección de las necesidades formativas se realizan por parte de la dirección atendiendo a diferentes agentes sectoriales y profesionales como las federación de cofradías de pescadores las organizaciones de productores de pescado de altura los de ondarroa básicamente

y personas interesadas que se dirigen a nuestras oficinas solicitando determinadas necesidades formativas por sus condiciones de trabajo y por las necesidades que se suscitan atendiendo

se definen desde la dirección de pesca la oferta formativa que va a tener lugar cada uno de los años teniendo en cuenta el número de administraciones competentes hay que considerar que en ocasiones nos toca como usted bien decía organizar y coordinar esta oferta formativa además de la que nosotros proponemos utilizar otras administraciones

que han contado con cerca de doscientos personas asistentes a modo de información también le puedo facilitar los que se van a dar en el dos mil dieciocho que ya están previstos

para cualquier sector marítimo profesional excepto aquellos que hacen referencia a

por tanto yo creo que la única forma de trabajar es atendiendo a las necesidades del sector y así nos lo hemos propuesto poder atender todas esas necesidades como el año dos mil diecisiete y tengo que señalar que todos estos cursos además se ofertan a coste cero para todos los asistentes

señora consejera usted sabe que los certificados de especialidad este año no se han ofertado usted sabe que

y que la respuesta que dan desde la escuela los trabajadores es déjenme los datos ya le avisaré cuando salgan está pasando el tiempo y estos cursos no se ofertan

que son complementarios a las titulaciones profesionales y son imprescindibles

y está obligado a controlar las caducidades a efectos de embarque

en su trabajo señora consejera para sacer el certificado de especialidad pertinente o renovarlo tiene que pasar por la escuela tiene que haber una oferta y en este momento usted sabe que esa oferta no se ha dado

está perjudicando a muchos trabajadores porque todavía la semana pasada llamamos a la escuela de pasajes y le voy a decir lo que me decía

ya lo recogemos ya les avisaremos tenemos una amplia demanda señora consejera

no pueden renovar sus certificados sabe usted que son obligatorios que hay caducidades que hay que renovar esas caducidades que los tienen que

entonces señora consejera usted que se manifiesta tan ansiosa reclamando competencias las que

resulta que una competencia que tiene usted para desarrollar no la cumple bien no atiende a las necesidades de los trabajadores están yendo a santander están yendo a denia

qué hacemos desde aquí para atender las necesidades de esos trabajadores la verdad señora consejera que es una pena que estemos en estas circunstancias y de esta manera creo que no se está atendiendo debidamente la respuesta que está dando el gobierno

la atención de las necesidades de aquellas personas que necesitan los certificados de especialidad usted no los está aportando esta dirección de pesca no ha ofertado los cursos para estos certificados obligados que tienen que

señora consejera yo le pido que por favor atienda esta necesidad nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

marinero de máquinas y marinero de puentes para el próximo año dos mil dieciocho formación básica dos cursos en bermeo dos en ondarroa dos en pasaia en el global maritime distress and safety system es decir curso asociado a seguridad en el mar

en formación básica completa y marinero pescador uno en bermeo uno en pasaia

otro en bermeo también analizándolo en dos semestres diferentes en marinero de puente uno en marinero de máquinas uno en embarcaciones de supervivencia y botes de rescate uno

estos son los cursos que se van a ofertar en el dos mil dieciocho ahora bien quiero recordarle que usted cuando

en algún momento decidió apostar porque esta formación no se diera de una forma y se diera

de subsanar cuando en un determinado momento esta formación no es reglada y se tiene que

le he citado todos los cursos que se van a dar este año con el objetivo de atender todas y cada una de las necesidades del sector pesquero eskerrik asko eskerrik asko tapia

andrea entre enero y febrero de este año se produjo la parada general de la refinería de petronor y en esa parada

se produjeron diversas reformas de importancia entre ellas la de la planta de coque

qué alcance tenía esa parada y si tenían conocimiento nos dijeron por escrito que no se tiene conocimiento del alcance de los trabajos que no existe ningún informe técnico al respecto y que la delegación territorial de bizkaia de este departamento desconoce lo que se está haciendo pedimos entonces

el alcance de esa parada y excusaron su presencia en este parlamento diciendo que

que la actividad de petronor es una actividad autorizada regulada y fiscalizada por las autoridades administrativas competentes y yo le pregunto si ustedes no saben lo que está haciendo petronor y petronor dice que ustedes le controlan mi pregunta es

un trato de favor en cuanto a la inspección y al control

de la parada técnica a la que usted hace referencia evidentemente las inspecciones técnicas posteriores para validar la situación en cuanto a

se han hecho en tiempo y forma usted conoce también que se tienen distintas calificaciones y en el caso de que haya habido algún problema

posibilidad de ser subsanados para una próxima inspección y tengo que señalarle que petronor se encuentra al día de todas sus obligaciones de realizar las inspecciones correspondientes de haber atendido a las subsanaciones y que en ningún caso se le ha dado un trato diferente

señora tapia me alegra de que hayan hecho su trabajo a pesar de que en marzo no sabían que tenían que hacer ese trabajo ustedes decían

obliga a que ustedes sepan todo lo que está haciendo la refinería pero aparte de eso tengo que decirle que la planta de coque que ha sufrido reformas en esta parada

y sin embargo entre dos mil quince y dos mil dieciséis ha sufrido siete paradas imprevistas

de polvo de coque que ha contaminado todo su entorno esto por lo que respecta a la planta de coque

a finales de dos mil dieciséis en dos mil diecisiete ya han sufrido siete paradas de emergencia y la turbina de cogeneración otras cuatro paradas en total las plantas

once parados no programadas y yo le pregunto si todo está en regla

por qué está sufriendo paradas de emergencia continuamente y por qué está contaminando su entorno con nubes de polvo que no tienen porque sufrir la ciudadanía de su entorno y yo le pregunto esta actitud de dejar hacer

tiene que ver acaso con que la persona que firmaba el escrito excusando su presencia aquí

exviceconsejero de industria y ahora director de relaciones institucionales de petronor

y ahora mismo asesor jurídico de la planta tiene que ver por ejemplo

esté contratada trabajando para petronor incumpliendo del decreto de transparencia de altos cargos que le impide hacer ese trabajo si no pasan dos años desde que cesó de su cargo yo le estoy preguntando

en relación con las puertas giratorias que hacen que buena parte de la gente que ha trabajado en industria y en el gobierno ahora mismo esté trabajando para petronor y que coincide que todas esas personas sean del mismo partido

está incumpliendo el decreto de altos cargos porque no ha comunicado esta circunstancia al departamento correspondiente del gobierno y ahora mismo

que tendrá que explicar gracias eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

andrea señor becerra cuando uno quiere mezclar todas las cosas usted desde luego es el amo de la barraca en hacerlo perdóneme la expresión en primer lugar las inversiones que haya hecho petronor en su planta de coque es una empresa privada por tanto puede dedicarle once mil millónes como ciento diez porque es su planta dos me hace

no soy especialista en esa planta y no la conozco por tanto

de privilegio en ningún caso que no existe ningún trato en ese sentido que no hay incumplimiento reglamentario ninguno que cumple

fallos que por tanto se encuentra perfectamente al día de todas las inspecciones necesarias

ahora bien como le gusta a usted mezclarlo todo también habla de personas que están trabajando allí y me dice que gran parte de la plantilla de lo ha dicho gran parte creo que además de tres gran parte seria que trabajan como cuatro pues creo que trabajan unos pocos más que cuatro el señor zudaira hace mucho tiempo que dejó de ser viceconsejero de industria

por tanto una cosa es que uría y menéndez haya sido contratado para petronor y la señora pilar urrutikoetxea también debe prestar sus servicios

no está contratada por petronor y usted lo sabe perfectamente por tanto

en cualquier caso la respuesta a la pregunta y usted sabe que el expediente se puede consultar

es limpio y no ha sufrido ningún trato de favor

no solo para este caso sino para todos los casos un decreto nuevo de inspecciones periódicas que regula la tramitación para que sea todavía más clara más accesible

en forma y de la manera más adecuada para que podamos hacer ese seguimiento y para que todos los expedientes

para que no exista duda en ningún caso de que se hacen las cosas bien lo sabe usted

de ver ese decreto de inspecciones técnicas porque evidentemente tendrá que pasar por una tramitación pública eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua

muchas gracias señora presidenta señora consejera tiene hoy usted un pleno va a ser la estrella del pleno al paso que vamos

indico que en virtud de la legislación vigente debía de haberse transferido hace cuarenta años la competencia de gestión de los puertos vascos de bilbao y de pasajes ambos considerados de interés general y nosotros lo que le preguntamos es si la señora consejera conoce

que dice que esos puertos son competencia del estado eskerrik asko damborenea jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

sí es cierto que hoy me toca responder a unas cuantas preguntas entiendo que es porque en el anterior pleno tampoco pude asistir

aquel plan tiene usted información pero no completa porque además de hablar de eso hable de otras muchas cosas hable de que el puerto de pasaia tiene una ubicación geográfica importante que tenemos que aprovechar hable de que

de nuestros puertos tanto el de pasaia como el de bilbao hacen que nuestra economía también mejore hable que teníamos que tener unos puertos que estuvieran de acuerdo

y con una proximidad importante a un hub logístico que se puede desarrollar en araba también dije que era necesario desarrollar una serie de

de la mano de otras instituciones competentes que habíamos hablado y habíamos conseguido un acuerdo para el desarrollo de la variante sur ferroviaria que esperaba que se cumplieran todos los acuerdos comprometidos también hable de todas esas cosas y evidentemente

lo que usted dice pero también el estatuto de autonomía en su artículo doce punto ocho señala que abro comillas corresponde a la comunidad autónoma del país vasco la ejecución de la legislación del estado en materia de puertos de interés general

pero como se la suele reservar en un uso indiscriminado y abusivo entendemos que también a ello se puede sumar lo que dice el nuevo reglamento europeo

que define tres figuras importantes que son la autoridad competente el organismo gestor de puertos y prestador de servicios portuarios

supone una oportunidad para que se otorgue a la comunidad autónoma esta gestión por tanto basándonos en lo que dice el estatuto de autonomía y además en lo que dice el nuevo reglamento europeo

se puede proceder a que la gestión de los puertos de pasaia y de bilbao sea ejecutada por este gobierno eskerrik asko eskerrik asko tapia

también espero que se cumplan todos los acuerdos que ustedes y nosotros

para ello en algún caso hará falta que haya presupuestos del estado para el año que viene así que aplíquese el cuento

en la página web de su departamento de su departamento en referencias normativas

y dice que ya se transfirieron los puertos hace treinta y cinco años hace treinta y cinco años

es que desde entonces aunque tenemos capacidad normativa ejecutiva legislativa de desarrollo capacidad plena no tenemos

supongo que porque durante treinta y cinco años el gobierno vasco ha decidido que la prioridad es esa que donde tiene competencias exclusivas

pero le voy a decir más ustedes hace un mes nos han remitido

incumplimientos del estatuto de gernika en materia de transferencias y en la ficha tres está la de los puertos bilbao y pasajes y le voy a decir lo que dicen

en el artículo del estatuto que dice cuáles son nuestras competencias y usted ha hecho la trampa antes también como lo hacen en este informe porque este informe que dice dos son los puertos de interés general el de bilbao

etcétera etcétera etcétera y lo que dicen ustedes no dicen

previa modificación de la normativa por el estado se reclamarían funciones y qué dice más adelante usted no cita el artículo diez punto treinta y dos dice no

ejecución de legislación ejecución de legislación no gestión de ningún tipo

y qué viene a decir su propio informe por ello en los términos actuales no se cumple el criterio estatutario para su transferencia entonces yo solo le quiero hacer una pregunta es decir este gobierno se va empeñar en denunciar como

van a seguir engañando a la ciudadanía diciendo el estatuto no se cumple

pero dígalo pero a qué viene a decir que hace cuarenta años teníamos que tener esas transferencias

a qué viene eso no necesita hacer por qué tiene el empeño en devaluar el estatuto de gernika y en decir que se incumple esta es la ficha tres del informe del gobierno

yo solo les pediría un poco más de lealtad con el estatuto de gernika eskerrik asko damborenea jauna tapia andrea zurea da hitza

creo que la ficha tres hacemos referencia pero cuando hay muchísimas más fichas y muchas transferencias todavía sin transferir quien está devaluando el estatuto es precisamente el gobierno del estado que

se empeña en no cumplirla y cuando hablamos de puertos de interés general es cierto no podemos asumir del puerto en sí mismo pero sí la de su gestión que es lo que estamos diciendo y si ustedes son capaces de leer la ley de una forma flexible cuando les interesa leámosla en este caso porque dice cuando el estado no se reserve su gestión directa pues léanla la ley de una forma flexible dejen que la gestión directa

porque se puede hacer y porque además la propia normativa europea está diciendo que así se haga cuál es el problema por qué hay algunas leyes que se cumplen a rajatabla

y además las tratamos de leer de la forma más estricta quien está devaluando de verdad el estatuto
no es este gobierno señor damborenea y usted lo sabe perfectamente eskerrik asko eskerrik asko

sí le respondí señora kortajarena lo que pasa que le respondí que no me sentía yo responsable

para poder juzgarlas continuando con la pregunta que me realizaba

para nada tiene que ver el discurso del señor maroto que era un discurso que todos conocemos y que desde luego nosotros no compartidos y tampoco lo comparte el señor rementeria creo que el señor maroto se dedicó a criminalizar o a estigmatizar a un colectivo en concreto

que para nada es el mensaje que ha trasladado el señor rementeria

estamos comprometidos con el desarrollo humano con la integración social la igualdad y con los servicios públicos de calidad

que antes no existían más allá de lo que puede ser el de la salud o el de la educación

cualquier iniciativa discurso y campaña debería partir del reconocimiento de estos derechos y creo que así sinceramente todas las instituciones vascas lo hacemos

para nosotros algo importante es que nadie se tiene que quedar atrás sí pertsona helburu auzolanean y eso es el lema que este gobierno

lo que se tiene que hacer en el ámbito de las políticas sociales nuestro objetivo como el de las instituciones forales y municipales es la prestación de un servicio eficiente de calidad perfeccionando el diseño de las prestaciones y la interoperabilidad de los sistemas de información para garantizar que todas las personas que precisen ayuda la tengan y que cuenten con ella

e inclusivas que todas las instituciones llevamos adelante eskerrik asko

la campaña que está realizando la diputación foral de bizkaia yo no la he puesto en marcha no la controlamos nosotros

lugares públicos pero no es mi responsabilidad mi responsabilidad es la de gestionar los servicios públicos

que lo hacemos y lo hacemos todas las instituciones yo a veces creo que cuando ustedes asocian el control con la estigmatización o la criminalización es verdad no es el objetivo creo que sinceramente los sistemas de protección social tienen que estar protegidos también valga la redundancia y una forma de proteger es gestionar adecuadamente yo creo que

para desarrollar ese propio proyecto de vida y en esta cámara hemos aprobado por unanimidad iniciativas en las que se nos pide a los distintos responsables políticos

debemos hablar con responsabilidad y con datos objetivos para no alimentar los rumores y no hay nada mejor que

gestión protege y refuerza el sistema y en eso me mantengo mantiene y mejora la calidad de los servicios garantizando la atención que requiere la ciudadanía vasca y sinceramente creo que las afirmaciones que el diputado general hizo de

su compañera de gabinete la señora tapia le ha puesto en una situación difícil porque nos ha venido a decir que las instalaciones de petronor están

entre previstas e imprevistas pero ha dicho que está todo bien y claro a usted le queda el papelón ahora de garantizar que

para las personas y para el medio ambiente sea el mínimo posible claro petronor dispone de una autorización ambiental integrada como usted sabe donde se

condiciones que tiene que cumplir de funcionamiento para como digo evitar el impacto ambiental

la última inspección periódica que se hizo de esa instalación en junio de dos mil dieciséis reveló un nivel de incumplimiento medio o de cumplimiento medio que ya de por sí

petronor no cumplía ni en la protección de la calidad del aire ni en ruidos y otras emisiones

si en los treinta días de subsanación que se le daban a la empresa ha cumplido y ha subsanado aquello que no funcionaba pero yo le traigo

la cuestión referente al control ambiental que hace su departamento sobre

fíjense a pesar de que su informe de inspección periódica revela que petronor incumple en materia de protección de calidad del aire

ha ido desmontando todos los controles de calidad del aire o buena parte de los controles de calidad del aire que tenía esa refinería fíjese en el control de las emisiones en chimenea usted sabe que hay dos tipos de controles unos son continuos para hacer un seguimiento continuo de las emisiones de la chimenea y otros son cada dos años bueno

en los dos últimos años el informe anual que tiene que presentar petronor ha reconocido la propia petronor que ha superado los límites en cien ocasiones

y la planta de coque que nos acaba de decir la señora tapia que está perfecta

con las nubes de polvo de cuando fallan los cierres bien pues entre dos mil ocho y dos mil quince su departamento

eliminó siete parámetros y otros cuatro parámetros los pasó de continuos a cada dos años es decir justo cuando la refinería demuestra que está contaminando ustedes retiran los controles que permiten

que se refiere al control de las emisiones en la chimenea si hablamos del control de las emisiones

ustedes en dos mil diez cuando tenían que establecer las condiciones de la autorización ambiental integrada hicieron una cosa que para mí es insólita y es que le pidieron a petronor que les hiciera una propuesta de control

que les hiciera una propuesta a ver si estaba bien petronor les hizo una propuesta

pues bien esa propuesta incluía cuatro cabinas que dos son del gobierno vasco y dos son de petronor y aprovecho a decir que solo petronor tiene la llave es decir esas las controla petronor directamente bueno pues de esa propuesta de dos mil diez ustedes a lo largo de este tiempo le han eliminado un veinte por ciento de los controles es decir le preguntaron

cómo os controlamos cuando se lo dice petronor ustedes todavía se lo rebajan más bien

los que más me preocupan son los de unas sustancias que son los btx benceno tolueno xileno el benceno provoca leucemia

que para qué iban a controlar los btx total bien

esa cabina donde se había decidido que no se controlaban más los btx porque total nunca daba positivo llegó

máximo anual cuatro coma noventa y nueve el límite es cinco midió cuatro coma noventa y nueve a las tres de la mañana del dieciséis de noviembre de dos mil quince y sin embargo ustedes habían decidido

no solamente eso sino que de la página web borraron todos los registros de esa cabina no vaya a ser

este control si esta cabina estaba midiendo incumplimientos de tiempo atrás

estos datos los va recabando gente voluntaria que vive alrededor de la planta de la refinería

está preocupada por su salud y está preocupada porque entienden que la administración no está controlando a petronor no solamente tienen claro que industria no controla a petronor

sino que creen que medio ambiente tampoco controla la actividad de petronor

mujeres tengo que decir mujeres porque siempre tiene

mucho más mérito el tener que estar después de un montón de tareas después de tu trabajo después de

tener que ponerte en el ordenador de casa a mirar todas las noches cómo está incumpliendo la planta los límites de emisión tener que recopilarlo todo y tener que

que se está incumpliendo todo y ser ninguneadas esas personas por la administración cuando van con las pruebas y no se les hace ni caso

por su salud y por el medio ambiente que rodea ahora mismo a la refinería

ineludible que es la obligación de velar por ese medio ambiente y por la salud de esas personas ustedes tienen una red de calidad del aire que debería de servir no solamente para verificar que se está cumpliendo la ley sino para evaluar la calidad del aire lo están diciendo en su página web y sin embargo cuando ven que no se pasan los límites

áreas intermedias de afección a la salud de las personas

ni mide todos los contaminantes ni proporciona datos inmediatos algunos se proporcionan seis meses después

una emergencia de verdad y además no está entregando a salud pública

hacer su labor y luego le voy a interpelar al señor darpón al respecto también se dijo en su momento

saben cuántas veces se ha convocado esa mesa en estos últimos años una desde dos mil trece desde que se puso en marcha la planta de coque se ha convocado una sola vez y fue para tomar la decisión

de la estación que me he referido el ararteko en dos mil catorce

la preocupación no solamente sobre el comportamiento de su departamento sino de todos los departamentos en general del gobierno vasco respecto al control de petronor y mencionaba el ararteko al tribunal europeo de derechos humanos fíjese hasta donde nos vamos

derecho individual a la tutela ambiental a qué me refiero con esto

a medio ambiente que pueden afectar a la salud de las personas y privarlas

en su domicilio de su vida privada y familiar sin que se ponga en grave peligro la salud fíjese lo que le estoy diciendo que cuando alguien está en su domicilio

para proteger este derecho para que no solamente para evitar que alguien entre en tu domicilio sino para que la contaminación entre en tu domicilio

inviolable y habla de que las actividades contaminantes deben estar sujetas a un control administrativo y a una posterior vigilancia y que existe un deber de control público que tienen ustedes

para vigilar y controlar a esta actividad durante toda su explotación y sin embargo ustedes en contra de este derecho en contra de este deber de control público han ido desmontando

decía también el ararteko y no me voy a extender demasiado en que la administración ambiental vasca tiene que promover

mediante nuevos objetivos de calidad del aire y la inclusión de nuevos requisitos técnicos o valores límite es decir no vale con que ustedes digan ya se cumple la ley hay contaminantes como el tolueno y el xileno que no tienen límites ahora mismo establecidos y lo que le dice el ararteko es

para garantizar que petronor luego los cumpla decía también el ararteko y con esto finalizo

destacaba la importancia de que se constituya una mesa de seguimiento del control medioambiental de la actividad de petronor promovida por el departamento de medio ambiente y política territorial es decir su departamento con representantes de la industria pero también de las asociaciones vecinales o ecologistas en especial de aquellas surgidas y ubicadas en su entorno y yo le tengo que decir

ambiental de esta instalación y qué han hecho ustedes para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente limpio y qué han hecho ustedes para garantizar que esa mesa de acuerdo institucional que pedía el ararteko se haya puesto en marcha y funcione

me interpela usted sobre si tiene intención el departamento que dirijo y leo textualmente de exigir a petronor el cumplimiento en materia de emisiones en todo momento a fin de proteger la calidad del aire que respira la ciudadanía de los núcleos urbanos circundantes

el departamento de medio ambiente como conoce usted perfectamente

y por procedimientos tasados por tanto no es que tengamos intención de exigir a petronor el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas

es que se le ha exigido en el pasado se le exige en el presente y se le va a exigir en el futuro

y no solo se le exige sino que se controla

como sucede por cierto con el resto de actividades industriales o de otro tipo sometidas a autorización ambiental porque efectivamente la finalidad esencial

es la de evitar al máximo que dichas actividades afecten a la seguridad y a la calidad de vida de la ciudadanía así como la preservación del medio ambiente natural

ha hecho usted referencia a las observaciones incluidas

del año dos mil dieciséis y se las voy a explicar pero tendrá que admitir que su propia existencia es la demostración de que la viceconsejería de medio ambiente actúa con eficacia

y control de la contaminación siguiendo los procedimientos establecidos hay que señalar en primer lugar y dejarlo claro

cumple los estándares fijados en la normativa europea la incidencia que indica se refiere básicamente

que se registró en la estación de san julián de muskiz durante treinta minutos

del año dos mil quince treinta minutos a lo largo del año dos mil quince

pueda extrapolarse a todo el año que en esa estación arroja una calidad del aire calificada como buena

desajuste de las unidades de stripping que fue comunicado

por parte de la empresa explicando las acciones correctoras que se habían adoptado

tengo que decirle que desde la viceconsejería de medio ambiente se ha hecho un seguimiento concreto

con reuniones con la dirección de la empresa e inspecciones de las instalaciones en este marco y con el fin de mejorar los controles

un estudio para la posible implantación de alertas de temperatura

al objeto de evitar para el futuro incidencias como la indicada es decir

de la ausencia de impactos ambientales sino que también se ejerce un control posterior

de modo que una vez que la empresa nos envía el informe explicativo de la naturaleza y causas del incidente así como

y sus resultados todo esto vuelve a ser analizado por nuestros técnicos

se requiere la implantación de medidas adicionales por otro lado y al margen de la actividad habitual todos los arranques paradas y nueva puesta en marcha de las unidades de las refinerías son comunicadas a nuestro departamento al objeto de facilitar las labores de inspección y control que tienen encomendadas una información que por nuestra parte

en lo referido a las emisiones acústicas que también hace usted referencia la observación viene recogida en el acta de la inspección que se hizo a petronor

a todas las empresas de la comunidad autónoma en el acta se refleja que la modelización

no aportaba garantías plenas de que en periodos nocturnos se cumplieran los límites establecidos hay que señalar que los resultados de la modelización fueron tenidos en cuenta en el diseño

tal y como han comprobado los técnicos del departamento en este plan se incluyó

para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ruidos

tanto diurnos como nocturnos estas medidas correctoras

son las siguientes sustitución del silenciador del motor diesel

mejora de la insonorización de los secadores del aire en la planta tres en el área de conversión instalación de purgadores de pérdida cero

y encapsulamiento de la válvula de la zona denominada

en este sentido puedo informarle de que la última visita de inspección a petronor se produjo el pasado once de octubre de dos mil diecisiete

ambiental la información obtenida está siendo analizada actualmente por los servicios técnicos de medio ambiente para comprobar si las medidas han tenido el resultado deseado y valorar si se solicita documentación acreditativa a este respecto

complementaria a esta labor de prevención y control continuo hay que añadir los cambios incorporados a la autorización ambiental

incluyendo mejoras técnicas que redundan en un incremento de la seguridad ambiental que se han traducido en este ejercicio en once resoluciones resultado de un exhaustivo trabajo técnico en resumen

que le he comentado y dado que en el entorno de la refinería de petronor se cumplieron los objetivos de calidad del aire dos mil dieciséis

no creo que pueda ser puesta en tela de juicio la labor del departamento de medio ambiente no ya su intención sino su trabajo efectivo

molestas o contaminantes y para asegurar la salud de la ciudadanía y la preservación del medio ambiente señor becerra confía usted en los técnicos del departamento de medio ambiente

y tenga usted la absoluta seguridad de que los técnicos del departamento no tiene instrucciones de rebajar

de lo que es legalmente exigible a las empresas en función de los procedimientos y normativas que tenemos que desempeñar en el departamento como consecuencia que le he dicho en mi intervención

yo confío en la gente profesional que está en mi departamento

porque debo de confiar porque son funcionarios públicos y porque además por supuesto

cómo tienen que hacer su trabajo y garantizar la seguridad de la ciudadanía eskerrik asko arriola jauna becerra jauna zurea da hitza

yo también confío en los técnicos de medio ambiente de su departamento los he defendido recientemente en esta tribuna en lo que no confío

fíjese lo que le digo cuando una empresa tiene setenta paradas

en dos años tenemos que plantearnos que igual no está funcionando bien y no es lo mismo controlar una instalación cuando está en un régimen normal que cuando no

y petronor por mucho de que nos haya dicho la señora tapia no está funcionando bien y eso tiene una incidencia enorme y directa sobre la calidad

establecieron unos controles para un funcionamiento normal de una refinería pero es que petronor no está funcionando bien y claro usted me dice

claro si los miden sí pero es que ustedes han quitado parámetros de medición ahora mismo fíjese que en la chimenea no se puede detectar

son las dos sustancias que activan el plan de emergencia exterior de petronor es decir ahora mismo no es posible saber con sus últimos recortes de controles si en las chimeneas de petronor van a salir esas dos sustancias que son las que pueden matar gente

y he demostrado con datos de que petronor ahora mismo no está teniendo por lo menos no está teniendo

cien superaciones de los límites usted me ha hablado de uno yo le hablo de cien en dos años en dos años claro que los técnicos de medio ambiente harán su trabajo y mucho más que van a tener que hacer van a tener que ampliar la plantilla al doble

me habla del ruido del control de ruido fíjese ni el ayuntamiento de muskiz ni el de abanto tienen sonómetro y ustedes tampoco

o a una empresa que lo mida el día que le diga petronor cómo no va a cumplir petronor

de ruido la gente lo que quiere es que alguien vaya a medir por la noche el ruido y no cuando diga petronor que hay que medir el ruido

a desmantelar una parte del control que existía en su momento

incompletos porque los han ido desmantelando y el señor darpón cuando le pregunte si tiene afección petronor por la salud me dirá no con los datos que me da medio ambiente no la tiene claro me lo va a decir a que sí entonces

están fallando en la protección del derecho inalienable de las personas a vivir en un medio ambiente sano y saludable

pero la realidad es que a día de hoy a día de hoy esta planta no está funcionando bien

sufre esas afecciones y algo habrá que hacer en el gobierno y algo tendremos que hacer en este parlamento para que eso no sea así

a hacer de este asunto como dice la señora tapia mezclar unas cosas con otras pero la realidad es que el control

sanidad mira otra interior mira otra tendremos que empezar a asumir que el impacto que tiene una planta de este tipo

es tan grande y el impacto que tiene en las personas es tan grande

si cumple o no los límites de emisión porque como he dicho hay muchas sustancias que emite petronor que no tiene límites de emisión marcados por la ley y esto es muy importante porque esas sustancias son precisamente las más peligrosas sustancias que pueden generar cáncer que pueden generar leucemia no tienen

se cumplen los límites legales claro de las sustancias que los tienen las que no los tienen qué hacemos con esas sustancias qué hacemos con la gente qué le décimos a la gente

mire señor becerra yo le agradezco la preocupación que manifiesta con el medio ambiente y con limitar los impactos de las actividades humanas en el entorno natural pero

se exponga en esta tribuna yo se lo he dicho nosotros actuamos en base

reglados no podemos inventar los límites donde no existen ni exigirlos cuando no están recogidos en las normativas en los procedimientos

porque no podemos tenemos una limitación tenemos que actuar en base

compartiendo la preocupación por el medio ambiente no es deseable que incurramos en alarmismos injustificados que

las labores de control que se vienen haciendo en esta empresa o en cualquiera de euskadi y usted

porque yo le digo y le insisto los técnicos del departamento no tienen instrucciones de cómo tienen que hacer su trabajo

y en base a su trabajo yo estoy tranquilo en la medida que ese trabajo me garantiza en base a las mediciones que hacemos que estamos perfectamente

los límites de la normativa en calidad del aire en el entorno

no lo sé aquí para torear el toro

será que nuestros técnicos no lo están haciendo bien no será que yo lo estoy haciendo mal y los técnicos lo están haciendo bien seamos un poco sensatos en ese sentido

atengámonos a las reglas del juego todos sabemos

que una empresa dedicada al ecodiseño por ejemplo y los impactos

pues mucho mayores eso es así de claro y esto se hace también por supuesto con petronor todos sabemos que la calidad del aire en el

no es igual que la que se puede registrar en la cumbre del gorbea claro lo mismo que no es igual la calidad del aire de la cumbre del gorbea que la que puede estar en el centro de nuestras ciudades en base al tráfico

pero aquí de lo que se trata es de garantizar que no se alcancen nunca los límites que no pueden sobrepasarse de ninguna de las maneras y en el caso de los núcleos urbanos que rodean a petronor

no se superan afortunadamente como tiene que ser no se superan señor becerra entonces en fin reconozcámoslo no como si fuera algo no es así

esta actividad está controlada y la buena forma del sistema de control funciona y nos dan unos datos que nos permiten

lo que estamos diciendo los datos ofrecidos por las estaciones de medición y control circunstantes cumplen sobradamente con los objetivos de calidad del aire

en el país vasco cuyos registros están evaluados al completo exigir el cumplimiento de la normativa a las empresas y asegurar la salud de la ciudadanía y la calidad ambiental es una de las misiones que tiene este departamento y en el caso concreto

esta misión se realiza y entiendo yo hasta día de hoy con garantías plenas en función de los resultados que tenemos de las mediciones oportunas

yo creo señor becerra que con datos objetivos cuestionar la función y la labor que hace el departamento de control concreto de esta empresa

las mediciones oportunas el trabajo concreto para llevarlas a cabo sin duda son cuestiones de relevancia

de valor y técnico que yo respeto

usted dice aquí que confía pero por otra parte va dejando usted un rastro de desconfianza

ni al departamento de medio ambiente en una labor que entiendo yo es encomiable

señor arriola yo se lo digo de entrada yo confío en los técnicos en el gobierno un poco menos también se lo digo ahora me explico kutsadura mundu mailako heriotza ez naturalen lehen arrazoia da

señor otero me pregunta sobre qué opino sobre la falta de fiabilidad de la red de calidad del aire de euskadi

le voy a dar una certeza sé que es fiable sé que es fiable y creo que

la red de control de calidad del aire está integrada por cincuenta y tres estaciones fijas que

euskadi miden en tiempo real los principales contaminantes los rangos que nos permiten

es una red tupida que se complementa además con seis unidades móviles dos de ellas diseñadas especialmente para captar compuestos orgánicos volátiles

un análisis estadístico que nos permite ver cómo estamos en comparación con los valores establecidos

todos los datos de las estaciones que están supervisadas por técnicos del departamento y además son mejoradas

es verdad que alguna instalación puede sufrir a lo largo del año alguna avería puntual o estar

pero la fiabilidad de la red y los resultados que ofrecen creo que están fuera

de hecho la intensidad de captura de los datos y la cobertura temporal de su obtención

los informes derivados de estas mediciones es que la calidad del aire es buena

delante de las narices usted me habla que la calidad del aire es buena y que la red es buena yo le recuerdo lo que decía ecologistas en acción el año pasado en su informe sobre

dos mil quince hay que notar que un tercio de las estaciones han registrado porcentajes de captura de datos para algún contaminante inferiores a los mínimos establecidos por la normativa

de la información de partida y esto no es algo que lo digan los ecologistas radicales

en el informe anual de la calidad del aire que emite su departamento donde podemos ver que los problemas de datos no son puntuales sino que para por ejemplo las partículas en suspensión pequeñas dos coma cinco la estación de algorta llega a un porcentaje de captura de datos del cincuenta y ocho por ciento

o la de zumárraga un cincuenta y tres cuando por norma que usted

o sea que usted me acaba de decir aquí que estamos por encima de los estándares europeos y resulta que no estamos ni cumpliendo

la normativa estatal desde luego así no sé si vamos a llegar muy lejos porque además

es tan sencillo como que usted mire esto se dé una vuelta por los medidores el otro día se lo enseñé para durango esto es para gasteiz ayer

claro entre otras cosas lo que nos está pasando es que cuando la calidad de aire empieza a ser mala los medidores dejan de funcionar

fallan casualmente una y otra y otra vez y no solo eso

sino que además hacemos una calificación completamente subjetiva de la calidad del aire en la que ponemos los parámetros como muy bueno bueno y mejorable cuando tenemos por ejemplo la agencia medioambiental de estado unidos

moderada y no admisible lo que en estados unidos es no admisible aquí es mejorable

y nos está pasando que con el caso de durango no estamos cumpliendo las guías que nos marca la organización mundial de la salud que nos dicen que estamos por encima de los parámetros

un porcentaje del ochenta y cinco por ciento en los tiempos de toma de muestras para poder validar el año dos mil dieciséis que está acabado que son los datos que tenemos

partículas pe eme diez noventa y cuatro partículas pe eme cinco noventa por ciento monóxido de carbono noventa y cinco por ciento ozono noventa y cinco por ciento es la media lógicamente cumplimos muy por encima de los estándares europeos al margen y puntualmente que me puede decir usted una cosa o me puede decir la otra y sobre el tema de durango sí que

de la estación sobre partículas dos coma cinco que se publican en la

y durante unas horas no se publican más registros porque

se produce una evaluación por los técnicos de medio ambiente para conocer qué es lo que ha ocurrido y determinar el valor final o determinar en su caso si hay algún error técnico en esa estación y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos pero lo que hay que tener en cuenta siempre en el caso de las partículas pm dos coma cinco el valor límite que se refiere

promedio anual de veinticinco microgramos por metro cúbico de aire por media anual la normativa no establece valores en periodos de corta exposición como puede ser una o seis horas en consecuencia hablar

preocupante y muy peligrosa parece un poco o muy bastante exagerado en este caso cuando estamos hablando de una situación que estamos evaluando por parte del departamento y cuando sabemos que la referencia de las particular pm dos coma cinco siempre se refieren a promedios anuales no a una hora ni a dos por lo tanto todos estamos

la calidad del aire del país mejorar también los controles eskerrik asko arriola jauna

bueno en estos días se cumple prácticamente un año

de esta legislatura tenemos un año y es hora de hacer balance por lo menos esa es nuestra opinión

y sobre el que interpelo a la consejera es el balance sobre la consejería de educación como voy a enumerar cosas que no van bien y es para lo que le he preguntado a la consejera cómo piensa mejorar la situación

la ley de formación profesional está en marcha y será esperemos que aprobada

en la legislación del país vasco porque hasta ahora no teníamos ley de formación profesional luego

presupuesto pone de relevancia la complejidad de la materia que tratamos y por tanto lo hice ya en la comisión quiero felicitar no solo a la consejera sino a los viceconsejeros

que han participado en esa labor ahora bien como una vez que le dije a la consejera

la crueldad de la política y sobre todo del ejecutivo

se espera de nosotros y se nos paga por acertar y el acierto durante este año en educación

a desgranarlas vamos a ver empezamos el año con el informe

le dedicó dos minutos en comisión en su comentario

es una piedra de toque porque si bien puede haber muchas otras evaluaciones esta evaluación

y nuestro grupo siempre ha dicho como decíamos en etxepare

euskara mundura nuestro escenario es el mundo y esta evaluación nos confronta con el mundo y quiero recordar aunque es penoso recordarlo que los resultados del informe pisa no solo fueron peores que el

sino que si los leemos a igualdad

a igualdad de isec con el resto de las comunidades estamos prácticamente los últimos y eso es penoso y es duro y da hasta un poco de lotsa un poco de vergüenza

y tenemos que recordarlo porque el año que viene no va a pasar más tiempo el año que viene volvemos a tener los exámenes

clases o un refuerzo de lectura muy parecido al que han puesto al que tenían ya puesto en castilla y león

la potenciación de las bibliotecas cosa que aquí no es así aquí las bibliotecas se están quedando sin personal eso en cuanto

luego vamos a ir al presupuesto nosotros no estamos pidiendo un presupuesto mayor sino es posible pero estamos pidiendo que con lo mismo

en hacer más y mejor con el presupuesto porque independientemente que lo leamos en referencia al peso que tiene en el conjunto del presupuesto

el uno coma nueve por ciento nada más y va a ser difícil que se cubran necesidades tales como

en qué otra cosa estamos en una situación no deseable digámoslo así

la financiación aquí en este parlamento a veces vemos el escenario como de buenos y malos el bueno es los buenos son la escuela pública

la escuela concertada y eso es de una injusticia de una injusticia que francamente a nuestro grupo le hace rebelarse

decisión de los padres ahora bien defendemos tanto la pública como la concertada el otro día en comisión tuvimos

una comparecencia de una escuela pública que tiene unas condiciones muy deficientes bueno pues si esa zona de san sebastián a la que pertenece los padres

para poder elegir libremente necesitamos potenciar esa escuela pública para que verdaderamente

entonces nuestra postura es a favor vasca que tiene dos modelos que son muy injustamente tratados porque contra lo que se dice aquí no es cierto que sean escuelas privadas los colegios privados solo tendrían que responder ante la ley y

en euskadi tienen que responder ante la administración a todos sus requerimientos a todas sus normativas a todas sus regulaciones igual que la pública con una diferencia que el setenta por ciento de la financiación se va a la pública y solo el treinta por ciento de la financiación va a la concertada y eso nos parece francamente una injusticia francamente para los padres

para todos y en eso no vemos que se aborde verdaderamente el problema luego antes he hablado de éxitos tenemos un éxito un éxito en euskadi del que tenemos que estar orgullosos que es la formación profesional dual que se enuncia por primera vez como tal y se reglamenta

la fp dual ha multiplicado cada año

prácticamente ha doblado el número de estudiantes en esta modalidad

por encima del noventa por ciento de los escolares que salen de la fp dual consiguen un puesto de trabajo y el dinero que la consejería dedica a la fp dual se ha mantenido plano

pues ahora no sé si llegamos a mil cien o algo así

en seis años el año pasado conseguimos nuestro grupo consiguió un reforzamiento financiero para la fp dual

qué otras cosas vemos que para nosotros son capitales en los que no el esfuerzo que se debiera hacer es decir que no están yendo bien vamos a ver el tantas veces mencionado

castellano euskera e inglés u otro idioma

pero resulta que en la última ope que tuvimos

de setecientos cuarenta plazas que salieron solamente cincuenta y siete salieron con inglés entonces no vemos el esfuerzo no lo vemos

nuevas plazas durante el mandato bueno según los sindicatos eso reduciría la temporalidad solo en un seis por ciento y aun así y todo dado que no está previsto un número demasiado amplio para el dieciocho no sé cómo lo vamos a lograr

referencia rápidamente a las inversiones y solo voy a poner un ejemplo la upv tiene uno millón de euros para el mantenimiento de sus instalaciones sabe cuántos metros cuadrados tiene la upv

tiene uno millón de euros para uno millón de metros cuadrados edificios como el hospital de basurto que además tendría que ser ayudado no solo por sanidad sino por patrimonio porque es una joya que tenemos que cuidar

en los que los de mantenimiento dicen a veces que es hasta peligroso ventanas flojas

en fin me gustará seguir desgranando en la siguiente intervención algunas de las cosas que vemos que no están funcionando pero sobre todo lo que es más
importante que no van a mejor muchas gracias eskerri asko bengoechea andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

egun on señora bengoechea el objeto de esta interpelación tal y como indica en su justificación aunque luego en su primera intervención ha querido enumerar toda una serie de cuestiones que no le parecen que van bien y que pretende seguir aumentando luego y que

cuál es el propósito de la consejera en relación con las medidas a tomar para mejorar la política educativa del gobierno vasco

nuestros pilares son sólidos y los resultados nos avalan nuestros indicadores así lo acreditan

la tasa de abandono escolar en el año dos mil dieciséis fue del siete coma nueve por ciento el mejor dato de todo el estado y por debajo de la tasa pretendida por europa para el año dos mil veinte de hecho ese dato se ha mejorado recientemente ya nos situamos en el siete coma tres por ciento y precisamente hoy la comisión europea en su reunión de gotemburgo

los retos futuros de la educación van a recordar que el objetivo de europa es alcanzar el diez por ciento

alcanzamos el noventa y nueve coma cuatro por ciento de escolarización en niños y niñas de tres años y el noventa y dos coma nueve por ciento de dos años duplicando en este caso al estado con un cincuenta y dos por ciento y muy superior a europa que se sitúa en un veintiséis por ciento si nos fijamos en la tasa de repetición de los alumnos de quince años tenemos un veinticuatro coma tres por ciento frente al treinta y uno por ciento del estado pero todavía lejos de europa eso sí que está en el doce por ciento

contamos con un sistema altamente equitativo muy por encima de la media internacional entre setenta y cinco y setenta y siete por ciento de nuestro alumnado está entre los niveles dos tres y cuatro

el nivel de educación superior entre la población de treinta a treinta y cuatro años alcanza el cuarenta y ocho coma nueve por ciento

son simplemente unos pocos datos que también contribuyen a establecer la foto de nuestro sistema educativo berriro esanez badakit hobetu behar dugula noski

dieciocho compromisos específicos liderados por mi departamento para la presente legislatura y asociados a todos estos compromisos se están desarrollando

es público está a disposición en el programa de gobierno a día de hoy llevamos desarrolladas cincuenta y nueve iniciativas y ciento noventa y seis actuaciones concretas asociadas que contribuyen como no puede ser de otra forma a la mejora de nuestro sistema educativo

ebaluazio berrikuntza eta ikerketaren aldeko apustua egiten dugu potenciamos la innovación en la creatividad educativa mediante el desarrollo de los proyectos de excelencia

aquí destacamos por ejemplo la nueva iniciativa global de formación el plan bizikasi contra el acoso escolar o el impulso de las competencias científicas

impulsamos la modernización tecnológica de la enseñanza seguimos desarrollando el plan de mejora de infraestructuras dos mil catorce dos mil dieciocho incluido dentro del plan renove de empleo y reactivación económica

y exportándolo como modelo de demostración hemos puesto en marcha la estrategia universidad empresa con el compromiso de extender la formación dual en la universidad el impulso de las aulas empresa universidad o la conformación de un nuevo clúster impulsando así el sistema universitario sobre los principios de auto exigencia eficacia y corresponsabilidad

la integración laboral de la juventud es una prioridad que requiere la colaboración de los agentes económicos y sociales

reprochándome que yo había hecho la interpelación en nombre de pisa y que habría hablado de muchas cosas en un momento he dicho bueno pues tienes razón pero me he quedado mucho más tranquila cuando he visto que usted

se ha extendido por todo el departamento o sea que tenemos un empate y le voy a decir otra cosa si he tenido que hacer esa formulación es porque durante

por la cosa que sea por las razones que sean y lo he tenido que formular así para que fuera aceptado bueno pues teniendo en cuenta que las dos estamos hablando de una mirada general sobre la educación usted

a ver es que es mi función yo no soy parte del gobierno yo no estoy aquí para aplaudir con las orejas y aún así todo al principio le he dicho que se hacen cosas muy buenas y no solo la he felicitado a usted

pero mi obligación es ver las cosas en las que se pueden mejorar y en las cosas que además lo que más nos preocupa es que ese camino de mejora

usted ha hablado de la inmigración nosotros le vamos a proponer algunos sistemas

para ver cómo abordamos este tema pero lo que usted no puede hacer es coger criaturas que tienen aquí sin saber ninguno de los dos idiomas

en medio de un aula que tiene ya un progreso habrá que hacerlo de otra forma pero ese modelo está fracasando usted habla de que viene a las

claro que sí se las agradecemos y las escuchamos

no solo comparece usted en las comisiones comparecen multitud de colectivos que nos expresan su frustración y su

disconformidad y a ellos también tenemos que hacerles caso también entonces por ejemplo

en comparecencias o en conversaciones personales sabemos que

que tiene en estos momentos la consejería es lograr el pacto escolar señora consejera malas noticias tiene usted enfadados a muchísimos miembros que van a participar

porque esas cinco mesas tienen unos temas y para empezar y desde

no están ni de acuerdo en los temas que tratar quieren hablar de la estructura del sistema y quieren hablar de la financiación del sistema usted lo sabe mejor que yo porque ha hablado con ellos y además pueden ser la federación de ampa de la escuela pública puede ser kristau eskola

muchísimos colectivos que tendrían que estar en esas mesas

que se supone que tendría que estar listo para la primavera que viene más o menos para el verano que viene lo veo sin zintzilikan porque solo para conseguir

va a tener que hacer usted un verdadero esfuerzo un verdadero esfuerzo de pensar y nosotros lo pensamos así

sea el que sea todos pierden pero todos ganan si usted proyecta una imagen de rigidez olvídese del pacto escolar en un pacto todos pierden y todos ganan y yo le aconsejo

en este tipo de cosas o lo plantea usted así o no hay pacto escolar lo último la ley de educación

año de legislatura porque tal como va el pacto escolar etcétera etcétera

me dirá usted que estoy haciendo un juicio de intenciones o que me estoy adelantando o que soy un poco casandra pero no vemos

aprobada esa nueva ley de educación pero no nos preocupa tanto sabe por qué porque con la actual mediante decretos mediante normativas

muchísimo no espere a la ley de educación por favor hágalo ya con la ley que en estos momentos está en vigor muchas gracias

baino pero todavía me sorprende más haciéndome

responsable de los resultados de una evaluación pero sí

cuando una de las principales amenazas que tiene nuestro sistema educativo es la última ley para la mejora educativa impuesta por su partido y en este caso impuesta por su partido que por otro lado

generado por toda la comunidad educativa tiene al sistema enfadado sí al sistema enfadado y pretende tener al sistema en una situación de indefinición

pero mientras tanto nosotros seguimos por nuestro camino seguimos avanzando pero si le sugiero que reflexione

usted me viene a preguntar qué voy a hacer pero sabe cuál es el denominador común del sistema educativo vasco

sabe qué es lo que más afecta influye y agrede al sistema educativo vasco y por tanto a la sociedad de euskadi

su invasión de competencias a través de la lomce de los recursos que nos están interponiendo sabe qué es lo que amenaza al sistema educativo vasco

ante nuestras becas y usted me viene a preguntar qué estoy haciendo para mejorar el sistema le rogaría le sugeriría que primero arregle evite en lo que está en su mano porque siendo una gran responsabilidad de su partido parte de los problemas

también vamos mejorando nuestros resultados en un futuro

no he querido incidir en pisa porque como no sabía tampoco exactamente por dónde iba

la enumeración de aspectos que ha ido señalando

no quería incidir exactamente en cómo estamos solucionando el tema de pisa no solucionando sino poniendo medidas para ir mejorando los resultados que no son simplemente unas notitas como usted dice sino que hay toda una iniciativa global de formación

por lo tanto es bastante más de lo que usted está indicando también usted ha hecho referencia a los presupuestos y que no llegaban para la subida de sueldos señora

en la comparecencia que además se adelantaba un dinero en el dos mil diecisiete que eran treinta y ocho coma cinco millónes lo que nos hacía todavía mucho mayor el porcentaje destinado a educación en inversión

respecto a la fp dual no voy a entrar otra vez en el debate que en más de una vez hemos tenido porque

ha tendido a reglamentar la formación profesional básica es anterior a al lomce y de hecho también parte de nuestro recorrido

usted ha hablado también de la ope las cinco mil plazas las cinco mil plazas es el máximo con seguridad jurídica que nos impone

es decir señora es el estado quien nos condiciona cuántas plazas podemos sacar en la ope y cuando usted habla de las inversiones en la universidad nosotros estamos cumpliendo estrictamente el plan universitario con gran esfuerzo

por parte de la universidad y por parte de la administración luego usted me ha hablado del plan escolar seguramente habrá muchas más cosas pero espero que ya tendremos más ocasiones de hablar

yo no sé de dónde se ha sacado la información me parece que está bastante equivocada

exactamente el procedimiento el proceso que se está llevando a cabo y que se va a llevar a cabo para conseguir este acuerdo por la educación desde luego hay cinco grupos trabajando y están trabajando y están participando todos los agente usted está muy equivocada no se preocupe ya tendrá ocasión de conocer al detalle

yo creo que le están mal informando la gente está enfadada

básicamente y respecto al hecho de que hayamos dejado la ley de educación para el final yo creo que

la importancia que tiene la educación para el país vasco requiere un acuerdo previo

qué sistema educativo queremos en el futuro y estar de acuerdo para poder establecer una ley entre todos no impuesta como se ha hecho en el estado eskerrik asko uriarte andrea

presidenta señoras y señores parlamentarios consejeros consejera

evolución del sistema de la salud y de la medicina

denominada de otras maneras está adquiriendo protagonismo

en ámbitos congresuales en las sociedades médicas y científicas

incluso en los congresos de derecho sanitario buenos y vimos recientemente tuvimos la oportunidad de comprobar en un reciente foro de la universidad de

de salud donde expertos de distintos ámbitos debatieron sobre el impacto de esta medicina en las organizaciones sanitarias

de la medicina personalizada la necesidad de adoptar un plan de medicina genómica

el futuro de la medicina de previsión y de las iniciativas políticas que en este tema están adoptando países de nuestro entorno también tenemos que decir que

las cortes en el congreso en el senado en el senado con una ponencia al efecto se ha puesto a andar en relación con los expertos que van a comparecer y que sería interesante también conocer cuáles sean sus conclusiones en relación con las estrategias que con el conjunto del estado en el consejo interterritorial se pueden ir adoptando pero también en el congreso en relación con

necesidad normativa alguna modificación en relación con las cuestiones porque son cuestiones muy complejas

de eso nos hablará el señor darpón está claro que es un asunto potente en la actualidad se proyecta al futuro se proyecta al futuro y a la atención del ciudadano

incluso en relación con las cuestiones y con el fin de

de impulso de las políticas del gobierno está claro que antes de poder traer aquí una propuesta poder traer una propuesta no de ley o una moción sí que es bueno conocer la opinión

la vinculación del departamento de salud con la denominada medicina de precisión

denominada medicina genómica medicina personalizada es decir pues bueno los nombres que se están dando pues para identificar este concepto la medicina de precisión supone no solo la personalización de la medicina

la prevención y los hábitos de vida en este terreno los avances tecnológicos suponen la mejor herramienta de soporte a la medicina personalizada

qué propuestas existen pues la propuesta de creación de una estrategia de estado sobre medicina de previsión llevada a cabo por sociedades médicas oncológicas

algunas otras también también hay una propuesta interesante de donde han participado muchos expertos propuestas de recomendaciones puesta en marcha de programas de promoción de la medicina genómica o sea que ya se ha dicho aquí que es fundamental también en todo esto

en un ámbito tan desarrollado como el de la salud y la asistencia sanitaria y de la investigación sanitaria como es euskadi pues razón de más para conocer ese camino que tenemos

de la innovación son herramientas fundamentales para potenciar los cambios que permitan al sistema sanitario adaptarse a la medicina de precisión sin que esta suponga un desgate para la sostenibilidad precisamente estamos hablando de lo contrario por otra parte se debe potenciar

porque tienen mucho que decir y hemos visto experiencias interesantes en las propuestas que me he referido antes

precisión la genética debería ser un componente esencial

diagnóstico para miles de enfermedades genéticas consejo genético diagnóstico precoz prevención en familias

pronóstica para prevenir muerte súbita cáncer ictus tratamiento personalizado es decir selección de la mejor terapia

investigación y desarrollo en beneficio de los pacientes y de las nuevas generaciones bien la medicina de precisión

predictiva preventiva incluso participativa se habla de ciudadanos

valor preventivo y de promoción de la salud en definitiva podemos afirmar que la medicina personalizada está cambiando nuestro mundo nuestra capacidad de entender las enfermedades la asistencia

los ciudadanos o con los pacientes además de ir muy ligada a lo que llamamos también empoderamiento del paciente en relación con estas cuestiones su información por otra parte y desde un punto de vista de financiación del sistema sanitario que lógicamente es importante hace años no existían recursos para

sin embargo la reducción de los costes en la actualidad gracias a los enormes avances de la tecnología ha permitido que la medicina genómica

y que la mayoría de los países de nuestro entorno hayan puesto en marcha planes para aplicarla

el diagnóstico los diagnósticos de cualquier enfermedad de base genética diagnóstico molecular en carácter hereditario o esporádico la farmacogenética la farmacogenómica evitar además con ello toxicidades predecir las respuestas terapéuticas un enorme número de complicaciones se producen hoy en día por la utilización de falsos fármacos para el tratamiento de su patología o de inadecuados fármacos la medicina preconcepcional preimplantacional y prenatal

muy rápido y se tiene que avanzar por ahí en relación con la neutralización de la enfermedad

los trasplantes el desarrollo de conductas preventivas

bueno esas son las cuestiones fundamentales que tienen que ver con la implantación progresiva de la medicina de precisión de la medicina genómica hemos hablado se ha hablado del continuo abaratamiento de los procesos de análisis y estudios ligados a la medicina de precisión efectivamente hay que avanzar todavía mucho más

hay que tener en cuenta una cosa fundamental son los datos estamos hablando de datos estamos hablando de gestión de datos estamos hablando de gestión de datos personales

personalizada de muchas personas y la propia dos cosas interpretación

la necesidad además de compartir la información la interpretación de todos esos datos

de manifiesto que es necesario incidir más sobre ella ya hemos visto que hay de alguna manera hay experiencias en europa hay experiencias en españa hay experiencias autonómicas bueno también

estrategia ris tres pues también hay en esos procesos de innovación junto con el programa europea horizonte dos mil veinte pues bueno hay en relación con

dirigida a las cosas en materia de salud pues bueno hay un camino que recorrer pero en ese sentido y con el fin de impulsar desde este parlamento y de conocer la

le interpelamos sobre actuaciones y medidas de gobierno en este sentido muchas gracias

bere gaixotasunaren kontzeptu genetikoaren arabera señor barrio debo reconocerle que yo no soy un experto en medicina personalizada

han empezado a trabajar para incorporar la medicina de precisión

las terapias con mayor probabilidad de ser efectivas dependiendo del contexto genético tanto del paciente

de los tejidos la medicina de precisión se conoce también como medicina personalizada o medicina genómica y se refiere fundamentalmente al tratamiento de las enfermedades

el cáncer supone un conjunto de enfermedades de gran impacto en términos de morbilidad y mortalidad en nuestra sociedad se estima que cerca de un cuarenta por ciento de las personas

en algún momento de sus vidas pero al mismo tiempo que se incrementa el número de casos nuevos de cáncer en este momento o el año pasado

casos nuevos también se avanza en las posibilidades de diagnóstico precoz y de tratamiento

que el cáncer se está convirtiendo en muchos casos en una enfermedad crónica desde el departamento de salud conscientes de la incidencia e importancia que estas patologías tienen estamos trabajando en la elaboración del plan oncológico integral de euskadi un plan centrado en las necesidades de las personas con cáncer para ofrecerles

y por tanto espero que pueda presentarse e iniciar su despliegue el próximo año tal y como anunciamos la semana pasada

de presupuestos el plan oncológico integral se basará en tres premisas

un modelo asistencial basado en la atención multidisciplinar del cáncer centrado por un lado en la promoción de la salud y su prevención y por otro en la mejor asistencia sanitaria de los pacientes con procesos oncológicos

en segundo lugar en un sistema de información capaz de identificar las necesidades de las personas con cáncer pero también capaz de medir los resultados de los tratamientos y su coste y en tercer lugar en el abordaje de la medicina de precisión al tratamiento oncológico

ekitea la medicina de precisión consiste no solo en diagnosticar la presencia de una patología oncológica

según el tipo de tumor y el estado evolutivo del mismo puede permitir también

en función de la respuesta a un tratamiento específico en una determinada persona en la medicina de precisión no se tiene exclusivamente en cuenta

como pueden determinar la respuesta al tratamiento como los cambios genéticos

puede condicionar la capacidad de respuesta a tratamientos de quimioterapia radioterapia e inmunoterapia entre otros es decir

a partir del análisis de sus modificaciones genéticas se van a poder diferenciar en subtipos y esta nueva clasificación permitirá a los clínicos predecir mejor su respuesta

es ya una realidad para algunos tipos de tumores y además es previsible

según vayan avanzando las investigaciones actualmente en curso los propios servicios asistenciales son conscientes de la gran transformación

en cuanto a infraestructuras tecnología terapias e incluso al modo de organización de los propios servicios

se precisarán cada vez más equipos multidisciplinares compuestos por profesionales de especialidades

como la genética la inmunología la bioquímica o la anatomía patológica profesionales con los que contamos en la sanidad pública vasca

y en las nuevas técnicas para participar en decisiones clínicas

de comités de tumores grupos de expertos encargados en analizar los pacientes con los tumores más complejos o que precisan la atención de diferentes especialidades también contamos con comisiones hospitalarias de farmacia y con una comisión corporativa

para la incorporación de los nuevos medicamentos más idóneos y eficientes de igual forma los centros sanitarios y también los institutos de investigación sanitaria

y ofrecer alternativas de vanguardia a los y las pacientes

aspectos éticos de seguridad y de eficiencia lo que permite evitar riesgos para los pacientes la medicina de precisión está facilitando nuevas formas de relación con la industria farmacéutica incorporando conceptos como el pago por resultados

que obtuvieran los resultados esperados todos estos aspectos deben redundar en beneficio de los pacientes y de la sostenibilidad en el sistema sanitario que como todos saben es uno de nuestros principales retos

está trabajando para reforzar nuestras capacidades en esta área y desarrollar la medicina de precisión

las diversas actuaciones que se han venido realizando en este campo incluyen también el desarrollo del biobanco vasco el refuerzo de plataformas científico tecnológicas

en los institutos de investigación sanitaria así como la creación de un grupo de trabajo actualmente vigente en medicina personalizada dentro del área prioritaria

y también estamos participando además de con el ministerio en el consorcio internacional de medicina personalizada

explicaciones están bien claro que esta iniciativa quería poner de manifiesto

potente donde las sociedades científicas donde los expertos en medicina

están poniendo las bases es decir ha llegado hasta tal punto que efectivamente tanto en el senado como

de propuestas finales y de conclusiones como en el congreso también en relación con una serie de iniciativas que tienen que ver con instar al consejo interterritorial de sistema nacional de salud con el consenso

los pacientes profesionales sanitarios una estrategia nacional

y un marco regulatorio sí me gustaría preguntarle por eso si

que puede ser buena esa estrategia y que el gobierno vasco estaría dispuesto a participar en lo que están reclamando vuelve a haber un reciente informe sobre propuestas en relación con la medicina de precisión que habla precisamente de que una cuestión básica

es la participación de los agentes implicados fundamentalmente los gobiernos y lógicamente este también en una estrategia conjunta en ese sentido ver si el gobierno vasco también estaría dispuesto a esa estrategia en relación con el avance de la medicina personalizada de precisión porque lo fundamental es estar en red en estos momentos cuando vemos cómo funcionan los avances en la investigación de la medicina de precisión

en relación con los actores del proceso a los que son llamados profesionales pacientes sanitarios investigadores en relación con este tema

esa estrategia de estado en relación con la medicina de precisión

el reconocimiento de la importancia de la medicina de precisión y que se está trabajando

también se desarrolla la medicina de precisión en otras

en otros sectores de la actuación sanitaria y de la salud por eso mismo yo creo que

de buscar la colaboración también a nivel europeo ya conocemos la implicación hay algunas otras comunidades autónomas que tienen programas más específicos ya sabemos

el proyecto genoma médico aquí estamos de momento con la actuación de los profesionales en la genética

en ese proyecto ris tres donde participa el gobierno vasco pero es posible que

traer una moción en relación con el impulso de la medicina de precisión que yo espero podamos

estará presente en el próximo plan oncológico integral de euskadi está presente en la estrategia ris tres en el ámbito de biociencias y es un campo para nosotros muy importante

y biocruces por una parte se ha trabajado en el apoyo a las infraestructuras necesarias por otra se ha invertido en la generación e integración de conocimiento

un activo esencial para el desarrollo de la investigación biomédica en este sentido disponemos del biobanco vasco

referente por su calidad gestión actividad y transparencia el biobanco facilita muestras para la investigación

asistencial como de investigación y participa en redes y proyectos europeos

abordan facetas muy importantes para el desarrollo de la medicina de precisión como puede ser el uso de datos clínicos ante nuevos escenarios tecnológicos y científicos por otra parte también estamos invirtiendo en la generación e integración del conocimiento

un mayor desarrollo e implantación en los sistemas sanitarios la investigación en medicina de precisión estamos de acuerdo es transversal y abarca también a otras patologías

profesionales del sistema sanitario de euskadi lideran cerca de treinta proyectos fundamentalmente sobre cáncer de mama próstata melanoma hematológicos

neurológicas obesidad retinosis pigmentaria y enfermedades raras todas en relación con la medicina de precisión

y los esfuerzos internacionales para tratar de responder al reto de la implantación en este sentido euskadi participó en la elaboración de la estrategia europea

y en su primer plan de acción y formamos parte del consorcio internacional de medicina personalizada

en la que tenemos mucho interés dentro de la estrategia ris tres de euskadi y se creó un grupo de trabajo específico que continúa con sus labores

de medicina personalizada con los activos existentes en euskadi

se encuentran los de los institutos seguro que conoce usted hay un informe

las experiencias internacionales fundamentalmente la que hay en estados unidos tanto el proyecto de medicina genómica que hay

de francia alemania y me parece que también de estonia y se recoge también lo que ha hecho el ministerio y lo que hemos realizado en cada una de las comunidades autónomas también está ahí nuestra experiencia con los grupos de trabajo nosotros no vamos a tener

en participar y poner nuestro conocimiento con el resto del ministerio o con el resto de las comunidades entendemos que es un campo que va a modificar

determinadas prácticas de hacer medicina la práctica de secuenciación del genoma

en el coste pero a la vez abre un campo completamente nuevo en el enfoque del tratamiento de las patologías y por lo tanto vamos a intentar subirnos desde el principio ahora mismo como usted ve

hay medicina genómica medicina personalizada medicina de precisión por lo tanto estamos todavía en un momento

consejeros compañeros y compañeras a veces problemas pequeños y limitados

nos permiten detectar problemas de fondo y sobre todo las tendencias existentes

hoy traemos a esta parlamento el caso del equipo de profesionales

han desarrollado actividades comunitarias en la comunidad escolar más de sesenta colegios ikastolas escuelas del sector público y del sector privado y más de seis mil escolares

han sido vistos revisados educados en salud

hoy en base a criterios de optimización de recursos y reestructuración han dejado de hacerlo las profesionales de enfermería realizaban parte de las vacunaciones en la comunidad escolar revisiones de salud de los escolares

hoy solo realizan vacunaciones en algunos grupos de edad

y de la propia comunidad escolar que ya algunos claustros algunos equipos directivos están solicitando

realizaban tareas de promoción de salud tareas comunitarias

en los distintos centros de salud se han desarrollado procesos de coordinación e integración de las profesionales que desarrollaban su actividad en el marco del programa

de los centros de salud fundamentalmente para no duplicar actividades estos procesos

en muchas ocasiones han reforzado las actividades comunitarias

repito evitado duplicidades los programas de salud infantil y escolar de nuestros centros de salud necesitan reforzar su perfil comunitario

en donde estos profesionales han sido en ocasiones o pueden ser

de algunos programas de salud pública en el marco de una verdadera estrategia de impulsar la promoción de la salud pero en gasteiz no ha sido así

otras están trabajando en la atención especializada o hospitalaria otras están integradas en centros abandonando las actividades comunitarias y la mitad del equipo sin mayor información siguen vacunando exclusivamente en la comunidad escolar no se les ha propuesto ningún reciclaje para

nos preocupa que algunos equipos directivos no tengan esta visión estratégica de que la promoción y la prevención de la salud es una orientación

y además de intentar sistemas de salud más sostenibles sin embargo algunos equipos directivos lo han entendido así

que se ha desarrollado poco a poco pues se ha hecho con éxito como la propia organización sanitaria integrada de ezkerraldea y enkanterri

de uribe se trata de que los equipos profesionales en los centros de salud

tengan suficiente autonomía y organización para su trabajo en equipo que los equipos directivos de forma vertical

y la actividad autonomía para organizar el tiempo para asegurar la calidad en las actividades asistenciales y también para asegurar un espacio y un tiempo suficiente

no asistenciales y se potencia la atención domiciliaria de calidad asignando un tiempo suficiente y las intervenciones comunitarias

entre las actividades asistenciales y las actividades comunitarias por ello es importante contar con la experiencia ya acumulada de algunas profesionales que han estado trabajando en este marco de actividad durante treinta años y por eso algunos

así lo han entendido y han integrado en los equipos de atención primaria estas experiencias del antiguo programa de salud escolar

y dieron valor añadido estas integraciones de profesionales en los equipos a las actividades comunitarias de los equipos y del conjunto profesionales como contagiándoles es muy conveniente coordinar e integrar bien estas dinámicas organizativas distintas es un tema sencillo aprovechar la experiencia acumulada en el sistema o ir a los profesionales

hacia un perfil comunitario no necesitamos un sistema de salud orientado a más tecnología a más medicalización de la vida necesitamos un sistema sanitario público orientado a la actividad comunitaria

orientado a la prevención y a la promoción de los problemas de salud

que permitan dedicar más tiempo a la atención domiciliaria y al trabajo comunitario parece que cada vez tiene más urgencia que el propio departamento de salud redefina su opinión sobre el rol de nuestras enfermeras y nuestros enfermeros en el ámbito

en el ámbito comunitario de modo que puedan coordinar bien su tiempo y su actividad con las nuevas necesidades que demuestran mejores resultados en salud usted sabe señor consejero que uno de los principios de la atención primaria debe ser conjugar una atención personalizada cada paciente

comunitaria sobre los factores determinantes de salud hablo de la comunidad escolar hablo de grupos de mujeres hablo de asociaciones de pensionistas hablo de colectivos de inmigrantes etcétera etcétera la importancia de que nuestros profesionales

detecten los problemas y trabajen sobre los determinantes sociales de salud impulsar la prevención y la promoción de la salud punto básico

punto básico del programa electoral del partido nacionalista vasco punto básico del programa electoral de casi todos nuestros grupos políticos

en estos pequeños problemas como es el tema de las profesionales de enfermería

después de treinta años de hacer trabajos de promoción de salud impulsar la prevención y la promoción de la salud insisto

que oriente y racionalice las actuaciones del sistema sanitario es fundamental además de fortalecer las estructuras de desarrollo local los equipos locales de salud que tengan que ver con procesos de empoderamiento civil para intentar colaborar

con los procesos de mejoría de salud creemos señor consejero que no es suposición lo entendemos así pero parecería

en función de supuestas racionalización de recursos

unos toman unas decisiones otros toman otras pero es obvio que en gipuzkoa

no se han tomado las mismas decisiones y en estos temas de integrar equipos equipos con culturas distintas que no digo que no sea complejo aquí

tengo un respeto absoluto tanto por los profesionales como por los gestores que dirigen osakidetza comparto con usted la autonomía que necesitan

me da la impresión que solo necesitan autonomía los problemas sindicales yo creo que necesitan también autonomía los directivos y que a veces aunque hay que tener un común denominador las cosas no hay porque hacerlas exactamente igual en amurrio que en irún conozco lo difícil que es gestionar el día a día de organizaciones de la complejidad y el tamaño de la de osakidetza

los trescientos sesenta y cinco días del año las veinticuatro horas en un ámbito tan delicado como el de la salud confío en su compromiso responsabilidad y saber hacer

confío y respeto la labor y las decisiones de la dirección de la osi araba la autonomía de gestión de la que gozan y considero que no puede ser de otra manera como le decía considero que la dirección de la osi araba tiene la potestad de decidir

en todo caso dado que es a mí quien interpela trataré de darle

efectivamente como bien ha dicho hasta hace unos meses había un equipo de profesionales que desarrollaba actividades de promoción de salud en la comunidad escolar de acuerdo con el programa de salud escolar

y cuando digo en su día y como usted y yo sabemos estamos hablando del curso escolar ochenta y uno ochenta y dos hace treinta y seis años

y el peso a usted y a mí que es cuando el equipo de salud escolar se instauro

a hoy la organización de los servicios sanitarios y las necesidades de salud de vascos y vascas han cambiado notablemente también el comunitario como usted sabe en aquellos años de los que estamos hablando y cuando se creó ese equipo de salud ni siquiera

puesto que se creó por ley en el año ochenta y tres tampoco existía la ley de ordenación sanitaria que data del noventa y siete no se habían transferido los recursos sanitarios del estado a euskadi no existían muchos de los actuales centros sanitarios ni teníamos programas de cribado

la atención primaria no tenía nada que ver con lo que hoy tenemos y para no seguir hablando de las organizaciones sanitarias etcétera muy importante

dado que este se aprobó en el año ochenta y seis cuando se constituyo el consejo asesor de vacunación infantil en aquel momento pues hace ya más de tres décadas

con los buenísimos objetivos de lograr la mayor cobertura posible en inmunización identificar problemas de salud en etapas precoces

y nuestros equipos sanitarios siempre han tenido claro el ámbito de la promoción posteriormente ya con la creación de osakidetza se implantó el programa de salud infantil

con enfermeras y enfermeros y la supervisión de pediatras y paulatinamente se ha ido asumiendo los objetivos de aquellos equipos iniciales mejorando las prestaciones este proceso ha ido llevando una organización paulatina del trabajo en aquellos equipos de salud escolar

han ido concentrándose en los centros de salud parte por enfermería parte por pediatría a través del programa de salud infantil con el buen objetivo entiendo yo que comparte conmigo de evitar duplicidades en la atención sanitaria infantil

sino que los equipos de salud escolar después de treinta y seis años se han ido adaptando de manera paulatina a las nuevas necesidades de las diversas osi

en la mayoría de las mismas no hay ya un equipo específico de salud escolar y estas actividades como la comunitaria están integradas en el conjunto de los profesionales que atiende a la población pediátrica las enfermeras y enfermeros

se asumen dentro del programa del niño sano en los centros de salud en mi opinión y estoy seguro que la comparto con usted es importante avanzar

más modernas eficaces y eficientes y sobre todo continuar atendiendo las necesidades de salud de la población que ha tenido siempre como es la comunitaria

y sobre todo identificar aquello que aporta un valor añadido para mejorar la actividad asistencial y no hacer por continuidad lo que llevábamos haciendo desde hace treinta y seis años de la misma forma y esto es lo que ha ocurrido en la osi araba con el equipo de salud escolar

se ha tenido en cuenta a los profesionales inicialmente el personal de salud escolar estaba conformado por cuatro equipos tres formados por

y una enfermera y un equipo formado por dos enfermeras es decir el programa contaba con cinco enfermeras y tres técnicos

los equipos de salud escolar activos en estos momentos solo intervienen en vitoria gasteiz como siempre ha sido ya que en la zona rural eran las enfermeras de atención primaria

finalmente la osi ha decidido mantener un equipo con tres enfermeras y un técnico en cuidados de enfermería para realizar la vacunación en los centros escolares y para mantener una relación estrecha

le daré una curiosidad que seguro que usted la conoce la actividad del equipo de salud escolar fundamentalmente era la vacunación de los equipos y curiosamente el año pasado

en este equipo actúa como coordinador de actividades preventivas y promoción de la salud desde los centros de salud

se ha consensuado con los profesionales que formaban parte del equipo de salud escolar y al resto dos enfermeras se les ha ofrecido

y a los dos técnicos en cuidados de enfermería a uno se le ha destinado a atención específica a niños y niñas escolarizados con necesidades especiales y otro otro destino también en la atención primaria el nuevo si no tengo yo mal la información

atención primaria y está encuadrado en el desarrollo del proceso

avanza se adapta a los nuevos tiempos a las nuevas necesidades

y asistenciales teniendo en cuenta el objetivo final que no es otro que mejorar la salud de los vascos y las vascas

comparto con usted plenamente la autonomía tanto de gestión de nuestros equipos como la autonomía en el ejercicio

pero la autonomía debe ser siempre así debe ser siempre así o sea no es cuando uno le viene bien o cuando no no vamos a abandonar la actividad comunitaria estamos convencidos de que es muy importante pero también estamos convencidos de que cuando una persona tiene cáncer

en ese momento no necesitamos actividad comunitaria necesitamos

y cualificación por lo tanto el sistema sanitario es un equilibrio de atención primaria que hay que reforzar actividad comunitaria promoción y prevención pero también

es verdad que con la promoción y la prevención de la salud no conseguimos evitar que con el envejecimiento la gente enferme y también hay que atenderles pero comparto mucha parte de su discurso

y no podemos mantener una organización después de treinta y seis años igual

y en este caso fundamentalmente lo que ha traído es más una queja laboral de los profesionales que estaban en ese equipo y que se han reubicado eskerrik asko eskerrik asko

señor darpon yo no traigo una queja laboral de los trabajadoras

hay sindicatos hay medios hay procesos de negociación para que cada cual

yo traigo un problema que usted ha mencionado que es qué es lo que en este momento a nuestro sistema le da valor añadido cómo vamos a estar en contra de que nuestro sistema necesita alta tecnología para algunos procesos diagnósticos y terapéuticos cómo vamos a estar en contra del poco tiempo que tienen el equipo directivo de araba teniendo el hua en proceso de construcción y con un nivel de complejidad importante

problemas de fondo por qué no han hecho en la osi araba como uribe

explicando a los equipos profesionales cuál es la situación que el programa de salud escolar tuvo su dimensión histórica y debe integrarse en los equipos de atención primaria con nuevas responsabilidades comunitarias que nadie les ha explicado no me ocupo de los problemas laborales en este momento y en estas circunstancias

de métodos de trabajo verticales que hay que modificar me meto con procesos de valor añadido como es como usted bien dice la dinámica comunitaria de los centros

me meto en que cuando hay unidades complejas que organizar y que coordinar se ponga en valor añadido insisto en el tema lo que creemos que es nuevo y que puede dar a nuestro equipo a nuestros centros de salud más prestigio delante de la población más prestigio delante de los colectivos sociales

delante de las comunidades donde vivimos usted sabe y yo sé que hay mucha retórica en estos asuntos todos nuestros programas electorales todos los planes de gobierno

y la prevención tanto en los presupuestos hemos hecho algunas enmiendas parciales sobre el tema

no generalizables al conjunto de los tres territorios pues demuestran insisto que hay algunos amigos míos directivos de la osi araba

creo que es muy sencillo explicar a la gente lo que quieres hacer creo que es muy sencillo reciclar

pero nadie puede explicar a la comunidad escolar que

son asuntos baladíes y nadie tiene que explicar

la revisión del niño y de la niña sana y la revisión de las actividades

son parte del equipo parte de pediatría parte enfermería parte del parque de técnicos de cuidados son actividades integrales donde hay que revisar

el valor añadido como usted bien sabe que el pediatra y el médico o la médico de familia da no quiero extenderme solamente quiero plantear que yo comparto que cambiar culturas es muy complicado

lo que se llama la resistencia al cambio hay muchos profesionales

de salud también que se les modifica la actividad profesional sin contar con su opinión y la resistencia al cambio crea problemas que ya están en la prensa

integrando en equipos de centros de salud y no metiendo a las compañeras de enfermería en lakuabizkarra me parece que están las cuatro que usted ha dicho

sois profesionales de enfermería y sabéis perfectamente no están integradas en ningún equipo de vitoria bueno ha dicho que efectivamente el conjunto de profesionales de enfermería tienen nuevas tareas en los equipos menos una que está en oncología

y otro contrato que se ha acabado y simplemente o la plaza se amortiza o se cambia quiero decir que ha habido de todo eso de pasar profesionales de enfermería aunque sean dos

aunque sean dos a la atención especializada y usurpar plazas a la atención primaria hoy no es de recibo aunque la interesada fue por propia voluntad

pero no a oncología y no otra que fue y está en la prisión de zaballa asunto

pero no sé si a ella le parece muy bien lo que quiero decir es que más allá de los derechos laborales

estamos de acuerdo estamos de acuerdo no sería de recibo que haga usted una moción como consecuencia de interpelación con este tema

sobre el modelo de atención comunitaria de nuestros equipos de atención primaria y el reconocimiento y la importancia que hay que darle porque coincidiré con usted seguramente coincidiré con usted o usted o yo tenemos información distinta lo comprobaremos

a mí me han garantizado que no se ha detraído ninguna plaza de la atención primaria

que usted ha nombrado se ha puesto otra enfermera en la atención primaria pero bueno lo comprobaremos porque uno evidentemente no puede estar en todo yo

araba tenga tiempo para gestionar su ámbito porque si no imagine yo en cualquier caso usted sabe que desde hace años el modelo se ha ido transformando y que son varias las osi que usted ha nombrado dos

yo no voy a hacerles perder a todos el tiempo nombrando las otras doce que ya no tienen un equipo de salud escolar también es importante conocer que no se han producido quejas ni por los padres ni madres ni por los colegios con la delegación de educación

y expresó su consentimiento al respecto se ha dedicado en cuidados de enfermería para niños escolarizados con necesidades especiales sanitarias que era un problema que teníamos y que tenemos que afrontar en el conjunto de los territorios de euskadi porque nos parece verdaderamente importante de hecho

y las direcciones de los centros lo estamos metiendo en las agendas de todas las osi

la experiencia que estamos llevando a cabo con las redes locales de salud ámbito comunitario ámbito municipal trabajo conjunto entre atención primaria salud pública

es muy bien recibido por los municipios es muy bien recibido por los profesionales de atención primaria y hay que poner también el tren en los carriles ahora coincidirá usted conmigo

recuerdo también alguna responsabilidad suya en la comarca barrualde y el discurso de la atención comunitaria es fácil de hacer y no es tan fácil de llevarlo estructuradamente y de forma mantenida

de medir su resultados y de estar seguro de que

en cualquier caso creemos que la situación actual presenta numerosas ventajas

el hecho de que el nuevo modelo evita duplicidades en las revisiones y un tema para mí

muy importante hay que intentar evitar que la población infantil asuma un riesgo de medicalización como la que ya tenemos en la población adulta

hasta ahí podríamos llegar el centro penitenciario

es una población más con igual derecho a la salud que usted y que yo y el centro de salud

desde un equipo de atención primaria que está en el propio centro de zaballa como debe ser y esta enfermera se ha incorporado

evidentemente se ha incorporado a la atención primaria y a actividades de promoción y prevención que en el ámbito penitenciario son todavía más importantes

desgraciadamente que fuera de esos centros laburbilduz uria jauna umeen osasunaren promozio ekintzak

y luego quiero finalizar diciéndole tenga usted la certeza que las actividades de promoción de la salud en la población infantil de álava están garantizadas solo faltaría es una actividad fundamental del equipo directivo de la osi

de los equipos de atención primaria de álava eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako hamazortzigarren puntua galdera josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

yo quería que usted me dijera después de dos mil trece cuando entra en

qué ha hecho su departamento para garantizar la salud de las personas de la comarca eskerrik asko becerra jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

vamos a hacer un repaso de sus obligaciones señor darpón mire yo

la carga contaminante que está autorizada a verter petronor cada año es

y trescientos cincuenta toneladas de partículas todos estos contaminantes cada año obviamente tienen unas repercusiones que son innegables

provocar asma puede provocar insuficiencia respiratoria y pueden provocar enfermedad

pulmonar obstructiva crónica fíjese este es el mapa de la margen izquierda

de la margen izquierda el sentido del viento es así y así cada cuadro marrón es un cincuenta por ciento más de probabilidad de tener epoc en la margen izquierda que en la margen derecha

fíjese petronor reconoce en el registro estatal de emisiones que cada año lanza a la atmosfera seiscientos setenta y cinco kilos de cromo el cromo

es un cancerígeno probado de pulmón este es el mapa de cáncer de pulmón de euskadi los cuadros en beige

que el resto de euskadi yo no establezco la relación simplemente lanzo los datos petronor también lanza a la atmosfera cada año cincuenta kilos de cadmio el cadmio es un cancerígeno probado de próstata

entre un diez y un veinticinco por ciento más de probabilidad de cáncer de próstata no en la margen izquierda sino en el entorno de la refinería que en el resto de euskadi

de esófago y de laringe este es el mapa de cáncer de tracto digestivo superior de euskadi el sentido del viento se lo pongo es así y así más de un veinticinco por ciento y hasta un cincuenta por ciento más de probabilidad de cáncer de tracto

la relación la tiene que establecer su departamento los técnicos de su departamento hay tres evidencias aquí la primera es

inevitable por parte de la actividad la segunda es que desde dos mil trece la refinería no funciona bien y por lo tanto este impacto que es habitual

y la tercera evidencia es que los datos que ustedes están utilizando para evaluar el riesgo como le he dicho anteriormente al señor arriola no son completos porque medio ambiente no

y yo no le voy a hacer a usted responsable ni de estos mapas como es lógico ni de no tener los datos pero la realidad es que sus responsables cuando han comparecido aquí en el parlamento

al malestar al bienestar de la población y nosotros así lo expusimos y así le dijimos a medio ambiente que creíamos que tenían que tomar medidas para que ellos

becerra jauna conocemos los mapas

por diferentes comarcas por diferentes municipios diferentes riesgos

y es una imprudencia hacerlo es en enfermedades que son multicausales

y decir que la mayor incidencia de cáncer de próstata que fundamentalmente el principal efecto es el envejecimiento

eso no es ciencia eso es bueno parlamentarismo algo barato con respeto

lo ha dicho el señor arriola no hace falta hacer ningún estudio científico para saber

y un aire mucho más saludable que en algunas zonas industriales de la margen izquierda o de otras áreas del país vasco eso es verdad pero es que si no hay que dedicarse al pastoreo

están controlados la pasada legislatura el departamento de salud y el departamento competente en medio ambiente en este caso

colaboramos para la elaboración de evaluación de riesgos para la salud con el objetivo de estimar posibles riesgos asociados

a nosotros como gobierno partido nacionalista vasco partido socialista que no enferme la población tenemos tanto interés como con su grupo no lo dude usted por supuesto que queremos mantener la actividad industrial de eso vivimos pero tenemos tanto interés en la salud de la población

de la evaluación global del estudio realizado que además lo conocerá se deducía que la situación de los niveles de emisión de los compuestos analizados es relativamente buena relativamente buena una de las conclusiones del estudio es que la situación buena por otra parte las concentraciones de los contaminantes legalmente regulados está por debajo de los límites establecidos y yo creo que también lo ha dicho el señor arriola

de lo legalmente establecido y luego yo no presumiría que la unión europea que es la que en este momento está marcando determinados rangos son unos incompetentes tendría cuidado

en esta materia pero tendría cuidado por otra parte la evaluación de riesgos por exposición

y metales para efectos crónicos el propio informe concluye que el impacto

muy bajo para este con valores medios muy inferiores a los establecidos

vigente entre las medidas adoptadas conjuntamente con el departamento de vivienda y medio ambiente cabe destacar que se han mantenido reuniones con ayuntamientos vecinos y vecinas y con petronor para evaluar las conclusiones de riesgos se ha trabajado para mejorar

de calidad del aire y estamos trabajando también con la dirección de atención de emergencias y meteorología para mantener la vigilancia y respuesta a las incidencias que pueda originar una afección a la salud por otro parte nos consta que petronor ha revisado sus protocolos

con sistemas de alarma para compuestos orgánicos volátiles por si fuera oportuno actuar inmediatamente en definitiva creo que los técnicos del departamento de salud y los que lo gestionamos realizamos lo que está en nuestras manos desde el cumplimiento de la ley

zure da hitza gracias señora

a este parlamento que no es nuevo que es el tema de la falta de pediatras en la atención primaria el consejero tuvo ocasión de responder a una interpelación sobre esta cuestión y en una repuestamente formulada por este grupo señalaba

actual para tomar medidas y para mejorar dicha atención por lo tanto le preguntamos señor consejero

medidas para paliar la deficiencia de pediatras en la atención primaria en nuestra comunidad autónoma

señora garrido en euskadi gozamos de una buena asistencia pediátrica no coja usted mis palabras entrecortadas en el ámbito de la atención primaria

y además usted lo sabe lo cual no quiere decir que no se pueda mejorar en esta línea trabajamos para mantener el modelo de atención pediátrica en la atención primaria

como usted ha dicho este tema no es nuevo pero no se olvide usted no es específico

si tiene usted dudas yo le invito a visitar las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular

y solemos compartir el tema de la pediatría comunidades

son bastante más bajos y a veces nos miran con envidia gaur ume eta gaztetxoak osasunari dagokionean

aquí hay problemas y es que usted los ha reconocido le he leído la respuesta textual a la pregunta que le formulé

hemos preguntado para cuando esa revisión pero es que es más es que usted en la interpelación sustanciada

pediatras en la interpelación que se sustancio sobre esta cuestión nos señalaba que

pediatras de atención primaria y hospitalaria más personal de enfermería de pediatría más técnicos del departamento de salud de osakidetza usted ya está reflexionando desde el año pasado

por eso le preguntamos por los resultados de esta revisión a la que usted hace referencia en esta respuesta a la reflexión a la que usted hacía referencia en este caso al señor uria en la interpelación

de los recursos de los resultados y de planificar medidas y alternativas por eso queremos saber si esta revisión se está realizando

si se ha realizado ya cuáles son esos resultados queremos información señor consejero no que nos responda con los datos de otras comunidades autónomas que yo me alegro de que aquí estemos mejor pero quizás aquí teníamos que estar muchísimo mejor de lo que estamos teniendo en cuenta también

es que somos la comunidad autónoma que tenemos un gasto más alto mil seiscientos sesenta y tantos euros creo que era si no usted ahora dice la

y que va a ir a más la falta de especialistas la falta de médicos y la falta de especialistas en pediatría por el tema de las jubilaciones es un tema que sí sí sí sí por el tema de las jubilaciones por el tema de que aquí tenemos dificultades también añadidas de retención de los profesionales que se forman porque se van a otros entornos en el que por ejemplo no tienen la exigencia del nivel del euskera que se exige en esta comunidad autónoma o por qué no decir de pediatras que se van también países de nuestro entorno problemas también de que los especialistas en pediatría ven mucho más favorable

la atención en los hospitales este es un problema también generalizado por lo tanto señor consejero es un problema que hoy está aquí y que el día de mañana se va a agudizar por todas estas circunstancias que le estoy yo señalando por eso señor consejero la pregunta simplemente

de revisión pues queremos saber cuándo va a culminar ese proceso si ya ha terminado o no

que preocupa más allá de decirnos que estamos mejor que en otras comunidades autónomas cuando los padres y madres aquí llevan a los centros de salud a sus niños y hay problemas en el personal pues lo que quieren es respuestas respuestas por la institución competente que es en este caso el departamento

señora garrido el departamento está analizando la situación actual está buscando alternativas que mejoren de un problema que no es específico nuestro y en el cual

muchas herramientas alguna de ellas el ministerio de una manera resumida le voy a

en dos mil diez cuando usted apoyaba al gobierno en atención primaria trabajaban doscientos setenta y tres pediatras hoy ahora están trabajando doscientos setenta y dos en atención primaria la natalidad ha disminuido solo el año pasado nacieron dos mil diecinueve niños menos que en dos mil diez

hoy el gran problema que tenemos es que el ochenta y seis por ciento de la población infantil está atendida por pediatras tenemos una distribución de urgencias de pediatría en los tres territorios

como no tienen pocos países del mundo sin pedir nada absolutamente accesibles la media de niños y niñas por cupo pediátrico población sana está por debajo del ratio considerado óptimo por la asociación española de pediatría la frecuentación ha ido disminuyendo hoy

pese al criterio de la asociación vasca de pediatría que le gustaría que todos trabajaran a la mañana formamos veinticuatro mir de pediatría al año un número superior a las jubilaciones previstas

o a francia donde no hay pediatras en la atención primaria

hemos solicitado al ministerio desde hace tiempo más de veinticuatro meses

y estamos esperando la respuesta en el último consejo interterritorial pusimos el problema sobre la mesa con aplauso por algunas comunidades del partido popular

y solicitamos la competencia de acreditar nuestras propias plazas comparto con usted la preocupación que tiene por el problema con lo cual no dudo que a partir de ahora contaré con un aliado más para que el gobierno de españa

a colaborar en la solución mientras tanto no tenga usted duda o sea no tenemos capacidad de influencia sobre el currículum universitario y el currículum mir en la formación de pediatría desgraciadamente

es absolutamente hospitalario y desde hace unos años los pediatras prefieren trabajar en su especialidades pediátricas que en atención primaria contra eso estamos luchando
en favor de los niños y niñas de euskadi eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako

apuesta sin duda por la promoción internacional de euskadi como destino turístico y por ello acudimos a varias ferias internacionales como se viene haciendo por otra parte desde hace años en la mayoría de ellas el gobierno vasco se sirve de la cobertura que ofrece turespaña este año y los pasados así fue

en que se participó el año pasado y será en dieciséis de las dieciocho de este año turespaña como sabe es un organismo público adscrito a la secretaria de estado de turismo

en su dimensión turística pero esa no es su única función para nosotros es fundamental la asistencia que ofrece a las agencias turísticas de las comunidades autónomas para su promoción turística internacional el valor de su promoción se refleja en las treinta y tres oficinas de promoción turística que tiene repartidas por todo el mundo con un personal profesional experimentado y conocedor de las claves de promoción turística apropiadas al país de que se trate y esa es la razón por la que a la mayoría de ferias internacionales acudimos con su colaboración y en razón del costo en lugar de con un stand individual lo hacemos con un stand propio en el espacio que reserva turespaña

la mayoría de los cuales se dedicó al espacio que las empresas vascas utilizaron para sus relaciones de negocio con turoperadores por tanto y respondiendo a su pregunta

no han decidido ir ahora junto a turespaña en la promoción turística internacional de euskadi

internacional que turespaña ofrece a las agencias turísticas de las comunidades autónomas una colaboración que no se limita solamente a la participación en ferias sino también a muchas otras acciones de promoción que se desarrollan a lo largo del año en distintos países presentación a prensa especializada workshops con turoperadores jornadas inversas en el destino

yo no tengo ninguna duda de ello está usted además en su perfecto derecho porque eso responde

puede defender con total legitimidad esa opción pero desde luego yo creo que ni en esta cámara ni en la sociedad vasca una mayoría de ciudadanos y ciudadanas se sienten representados por una promoción turística que se realice en estos parámetros

si no como más de una vez ya hemos debatido la fuerza de la marca turística

radica precisamente en una promoción una identidad y una imagen diferenciada

se ha quejado amargamente de que algunas denuncias sobre la masificación

nos asocian causando un daño irremediable a nuestra imagen con otros destinos de sol y playa

pues hombre yo creo que más nos asocia con peñíscola ir con un cartelón de spain

más cercano por tanto no solo por razones políticas o ideológicas por sentimientos

sino también por razones prácticas de promoción de un destino turístico que como dice la ley

entendemos que la promoción especialmente en el ámbito internacional

y no debe ser compartida con una marca que es una marca muy fuerte a nivel

colectivo de la opinión pública internacional proyecta una serie de imágenes sobre lo que es un modelo turístico absolutamente distintas y en algunos casos antagónicas a lo que debe ser

este año han ido a londres aunque en otras ocasiones se ha hecho de mano de turespaña en los años anteriores a londres no se había ido de mano de turespaña y

se ha vuelto a ir de mano de turespaña no es extraño porque también en su momento otras personas que están en su gabinete propusieron promover euskadi con aquel

yo le digo que se deje de meter en charcos y que haga una promoción turística de la marca basque country como debe ser que busque colaboración con nafarroa y con iparralde

debería saber es el claim que turespaña dirige a los turistas

no del marco de turespaña que establecía en su espacio de promoción en esta feria pero le diré más

suelen acompañarnos otras instituciones forales y municipales a este respecto usted no menciona no ha mencionado no sé si a propósito o por desconocimiento

ambas instituciones hicieron uso de los servicios de turespaña tanto en ferias pregúntele a quien era director de turismo con el señor garitano

previa a la capitalidad cultural europea su pregunta más bien parece obedecer a un prejuicio particular suyo que ya expresó este verano sin que nadie se lo pidiese

a hacerlo cuando reprobó que el partido socialista estuviese al cargo de la promoción y añadía y cito

esa tarea es más coral de lo que usted supone por más que mi departamento contribuya de manera importante a partir de la promoción de la comunidad autónoma de euskadi como destino turístico

necesita al partido socialista fuera del gobierno vasco más aun si lo que quieres expresar es un quítate tú para ponerme yo

con sinceridad señor casanova entre utilizar los servicios de turespaña para favorecer

o parar trenes al ritmo de la macarena que es lo que me alarma a mí no hay color en ningún caso eskerrik asko retortillo jauna